como también es contradictorio y sonrojante garantizar por ley el derecho a la vivienda y permitir que en araba bizkaia y gipuzkoa al menos mil ochocientos treinta y seis personas se encuentren en una situación de exclusión residencial y que entre ellas trescientos veintitrés duerman en nuestras calles a diario duerman en edificios y vehículos abandonados bajo los puentes en cajeros automáticos o en las plazas de nuestras ciudades y municipios bochornosa es la situación de bizkaia en general y la de ezkerraldea en particular

eh bildu también ha denunciado y para la que también ha planteado soluciones estamos hablando de personas que no solo carecen de vivienda que ya de por sí es grave

otro tipo de problemas asociados problemas de salud malas experiencias tras contactar con las instituciones y fracasos personales entre otros por eso

hay que actuar de manera integral es lo que siempre hemos propuesto y lo que hemos puesto sobre la mesa y lo que hoy también proponemos diagnosia dugu eta egoera

o propuesta que el pnv y el gobierno han planteado después de más de un año a la problemática de las personas que carecen de un hogar al problema del sinhogarismo en este cámara ha sido nula

porque considerábamos extremadamente urgente y necesario

viven en la calle o pernoctan en albergues u otros recursos residenciales tienen que ser atendidas hoy señoras y señores desistimos

demostrado el grado de compromiso cero no sé si a la señora arregi le parecerá suficiente que euskadi sea la comunidad que ofrezca

o que cuando se comparan las cifras de las personas que carecen de vivienda estemos por debajo de la media o que las competencias de ejecución recaigan en otras instituciones quizá con eso

nosotras a eso lo llamamos autocomplacencia jaurlaritzak eskumenak ditu kasu honetan eta

no es necesario invertir ni más esfuerzos extras ni más recursos humanos y económicos para conocer esta situación los estudios de campo y este tipo de investigaciones

sobre todo si se realizan con agentes del tercer sector social pero es que eso ya lo tenemos el último publicado hace dos años por eso

hay que terminar con el sinhogarismo y hacerlo además de una manera integral porque todos esos números y porcentajes tienen cara tienen nombre y apellido son esas personas que duermen en el pórtico de la iglesia de nuestro municipio son los dueños y dueñas de los cartones con los que nos tropezamos cuando vamos a un cajero automático a sacar dinero

digno pero que actuemos también en el ámbito de la prevención es necesario que tengamos en cuenta tanto a las personas que no tienen un techo porque han sido desahuciadas

itinerante y prevén salir por ejemplo de un recurso sanitario o de un centro penitenciario es imprescindible que esos hombres y mujeres no caigan

ese es el camino a seguir la solución no pasa por estudiar ni más datos ni más informes es hora ya de tomar medidas concretas

bigarrena bezain inportantea da por lo tanto pensemos de nuevo en un enfoque integral que contenga acciones y asistencia pero también prevención para evitar la exclusión residencial planteemos soluciones y medidas para que estas personas se integren en la sociedad para que esta esté

pongamos en marcha una estrategia participativa basada en derechos fundamentales como el acceso a la vivienda una estrategia práctica con objetivos realistas

en el segundo punto instamos al gobierno a que trabaje con las instituciones competentes con los agentes sociales y el tercer sector para que entre todos y todas

esa estrategia integral para cambiar de raíz la situación de las personas que no tienen hogar le pedimos además que esta vez lo haga en un plazo de tres meses ya no van a tener un año porque ya lo han tenido todo ello para atender e integrar a esas personas

la cara más extrema de la exclusión social son las personas sin hogar o en exclusión residencial personas que no tienen acceso a un alojamiento y por tanto

de titularidad pública o de organismos gubernamentales en marzo de dos mil quince

el segundo estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave

referido al año dos mil catorce fue elaborado con la participación de diversos ayuntamientos diputaciones forales

y distintas entidades sociales este estudio refleja la realidad actual de las personas sin hogar en los principales núcleos de población de nuestra comunidad autónoma

en datos de dos mil catorce doscientos noventa y siete en álava

de las cuales trescientos veintitrés fueron localizadas pasando en plena calle datos que evidencian la necesidad y oportunidad de establecer una estrategia para erradicar el sinhogarismo en euskadi

y los agentes sociales que intervienen en este ámbito se debe establecer una política global de atención a las personas sin hogar partiendo de un diagnóstico consensuado esta propuesta coincide además con las resoluciones veintiuno y veintitrés del pleno monográfico sobre pobreza y desempleo de siete de noviembre del parlamento vasco que a día de hoy están incumplidas también

se instaba en junio de dos mil catorce al gobierno vasco en una línea muy similar a la resolución aprobada en el parlamento

siguiendo el mandato del plan nacional de inclusión social también en dos mil diez el parlamento europeo aprobó una propuesta para acabar con el sinhogarismo en la declaración aprobada se pide a la comisión europea que desarrolle una ambiciosa estrategia para abordar la situación de las personas sin hogar y que ayude a los estados miembros a que hagan lo propio con arreglo a las orientaciones del informe conjunto de protección

aprobado en marzo de dos mil diez como parte de la estrategia de la unión europea a dos mil veinte un reto importante que requiere de políticas integrales para su consecución partiendo de las experiencias desarrolladas en otros países y analizando los datos más actuales sobre las personas sin hogar en euskadi nos encontramos ante una buena oportunidad señor consejero si es que hay voluntad política para hacerlo porque contamos con recursos en funcionamiento que pueden ser de ayuda como son lanbide y etxebide y con instrumentos de lucha contra la exclusión social

tenemos el decreto de seis de octubre de dos mil quince que regula la cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales así como los requisitos criterios y procedimientos de acceso a sus prestaciones y servicios

a la vez que establece las obligaciones de las administraciones públicas vascas

de la comunidad autónoma vasca también tenemos la ley dieciocho barra dos mil ocho para la garantía de ingresos y para la inclusión social y también tenemos

activa que debiera haber sido el principal instrumento para desarrollar la inclusión en euskadi y a la que ustedes

a desarrollar y ya anunciaron una reelaboración de este plan que tampoco han hecho y también tenemos

y la reciente ley de vivienda aprobada en este parlamento

tejido social que ha conseguido avances en la lucha contra la exclusión social los socialistas tenemos claro que para ofrecer una adecuada atención a las personas sin hogar y

se requiere de una estrategia perfectamente elaborada y corresponde al gobierno concretamente al departamento de empleo y política sociales liderar este trabajo pero eso obvio que también

y las personas afectadas por esta situación en base a lo expuesto redactamos nuestra enmienda del grupo socialista que finalmente hemos transado

con las enmiendas presentadas también por el grupo populares vascos y upyd

refiere a la enmienda presentada por el grupo nacionalistas vascos ustedes decían o instaban al gobierno que antes de que finalizase el dos mil quince presentase un informe sobre la situación de la gestión en la que se encuentre la estrategia

el dos mil quince ya ha terminado el gobierno y el propio consejero podía haber pedido a petición propia una comparecencia en este parlamento y además nos consta que ya han hablado con el para que de manera muy creo que bastante próxima empiecen a elaborar esa estrategia pero este gobierno ha demostrado que no ha tenido demasiada ambición en esta materia desde

así que esperemos que hoy saquemos adelante este acuerdo que colaboren todos los grupos de esta cámara y que nos tomemos en serio una realidad social que desde luego

eta estrategia berria gizarteratze aktiborako en el pleno monográfico celebrado el veintiséis

de mayo del dos mil catorce en relación a

de casi todos los grupos con representación en esta cámara pero hoy si hace una semana este grupo interpelaba

en una interpelación al lehendakari que finalmente respondió el consejero y portavoz del gobierno señor erkoreka en relación al cumplimiento del calendario legislativo y a los

hoy también tenemos que decir que asistimos a un nuevo

del gobierno vasco en relación a propuestas de resolución acordadas en relación a una cuestión

importante como es paliar situaciones de necesidad arbitrar medidas

y especialmente aquellas personas que están sin hogar y sobre todo un plan de inclusión activa una estrategia de inclusión activa para dar una oportunidad a estas personas por lo tanto es otro de los ámbitos en los que vemos claramente

la pasividad de este gobierno nosotros por eso a través de nuestra enmienda

intervinientes planteábamos que vista que las resoluciones

llevadas a la práctica y había pasado un tiempo prudencial desde el debate de ese plan concreto para hacer frente al paro y a la pobreza pues hemos considerado oportuno de nuevo

una serie de propuestas de acuerdos

en este ámbito que todavía no se han cumplido por eso hemos instado al gobierno a dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas en este debate sobre la estrategia integral a desarrollar por el gobierno para hacer frente al paro y a la pobreza e informar también al parlamento vasco del grado

de las mismas en el parlamento vasco pero claro esto no sería

que estos planes no se han aprobado y que tampoco sabemos nada del cumplimiento de otras medidas

en este plan especifico pues indudablemente la situación consideramos que es un tanto preocupante y por eso la conveniencia de que hoy haya un mandato nuevo en este parlamento en el que se le encomienda al gobierno vasco que cumpla las resoluciones acordadas

aprobatutako erabakiak la pobreza y la exclusión social desde luego son graves situaciones como también lo pusimos de manifiesto en el debate

bienestar de las personas cuando aumentan los niveles de pobreza

familias y esto ha sido una de las principales consecuencias de la crisis económica que hemos padecido y que ahora podemos decir claramente que estamos en la remontada de esa crisis económica aunque sin duda quedan muchas situaciones a las que

ondorio nabarmena izan direla pero la crisis económica no ha afectado a todas las personas por igual y

especialmente a las personas que estaban en una situación económica y de exclusión social a las personas que estaban en una situación de especial vulnerabilidad y también la pobreza se ha agravado en algunos sectores específicamente que tienen que ver con esos grupos más vulnerables y que ha hecho que los pobres sean más pobres y hayan aparecido o forma severa de pobreza que existían se

también hay que decir que la pobreza está ligada íntimamente a determinados grupos de riesgo como mujeres jóvenes

un apartado muy especifico en el debate y en las propuestas de resolución que aprobamos en este asunto

al mercado laboral y tener unos mínimos ingresos tenemos que decir que el sistema vasco de protección ha contribuido y de hecho contribuye a paliar y reducir las situaciones de exclusión garantizando unos mínimos vitales a aquellos

pero también creemos que el sistema luego vamos a tener otra iniciativa en la que se evidencia

muchísimos aspectos pero creemos como decía que este sistema es susceptible de mejorarse y hay que mejorar en relación

avanzar en la prevención y en la detección de estas situaciones con un sistema de alertas que permita detectar a las personas en situaciones de especial dificultad y en riesgo de exclusión que garantizar que en el sistema estén las personas que realmente lo necesitan y esto hemos visto que a veces no es así por eso hay que reforzar

estén las personas que realmente lo necesitan y otro de los aspectos fundamentales que tiene que ver con esa estrategia de inclusión laboral es la reinserción social laboral de estas personas por lo tanto los poderes públicos y el gobierno vasco tienen la obligación de adoptar medidas concretas

paliar o reducir los índices de pobreza y exclusión social

por la necesidad de desarrollar implementar políticas integrales cuando hablamos de las personas sin hogar estamos hablando de personas que no tienen

todo lo que tiene que ver con garantizar su alimentación la educación

en ese sentido sí me gustaría traer a este debate la referencia de la estrategia nacional integral para personas sin hogar aprobada por el gobierno de españa dos mil quince dos mil veinte

una respuesta integral con un marco integral de actuación a estas

muy interesante y que precisamente como en este ámbito ha habido una legislación concreta por parte del gobierno de españa creo y viendo que el gobierno vasco no ha hecho los deberes a día de hoy puede ser una importante referencia creo que es un documento que además

todos los aspectos que pueden abordarse y que pueden incidir en mejorar la situación de las personas sin hogar también con un análisis de los colectivos más afectados

sin hogar constituyen el rostro de la exclusión social y el más visible pero no solo tiene que ser el objetivo la reducción de las personas sin hogar y la asistencia a estas personas

que estas personas puedan reinsertarse en la sociedad y tener una oportunidad y por ahí me parece importante

y no tenemos que conformarnos con la cobertura de sus necesidades vitales que por otra parte tampoco es poco y la recepción de un subsidio sino que hay que

de ahí el enfoque de la inclusión activa y de la inclusión socio laboral de las personas más vulnerables por eso somos

con especiales dificultades de inserción laboral socio laboral y entendemos que hay muchos márgenes de mejora en los instrumentos que tenemos

entendemos que la transacción que se ha firmado recoge nuestra demanda que era de que se cumplieran las resoluciones y en ese sentido vamos a dar nuestro voto favorable y esperamos que de una vez ya por todas el gobierno vasco en un nuevo incumplimiento se ponga las pilas y

esas estrategias que a día de hoy todavía no se han elaborado eskerrik asko garrido andrea mistoa upyd maneiro jauna

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari buenos días lo cierto es que creo que hemos demostrado

sensible con aquellos ciudadanos en peor situación económica y social en aquellos ciudadanos víctimas de la exclusión social siempre hemos observado con especial atención la situación en la que se encuentran

las personas con bajos salarios las personas que sufren la precariedad laboral las personas que se encuentran en situación de pobreza las personas que

las personas que han sido durante todos estos años víctimas de desahucios y evidentemente también hemos sido siempre sensibles y hemos estado atentos a la situación en la que se encuentran

esta realidad y hemos estado atentos a los distintos informes y estudios que han tratado estos asuntos y como no podía ser de otra manera en un grupo de la oposición

y hemos analizado en profundidad si lo que ha venido haciendo este gobierno ha sido o no suficiente y si efectivamente este gobierno puede hacer más de lo que ha venido haciendo

donde reiteradamente por poner un ejemplo hemos venido pidiendo al gobierno un plan de lucha contra la pobreza infantil se trata por lo tanto de observar la realidad

ante el sufrimiento de miles de personas y en este caso concreto como no podía ser de otra manera nos preocupa sobremanera la cifra de personas sin hogar que malviven en euskadi durante los últimos meses han salido noticias en relación a la situación que viven estas personas

diferentes noticias hemos leído que la cifra de personas sin hogar no crece en euskadi a pesar del aumento de la pobreza pero que sin embargo se mantiene hemos leído que en dos mil catorce había mil quinientos trece personas durmiendo en albergues y pisos de acogida y otras trescientos veintitrés

cifras similares a hace dos años hemos leído que la renta media de las personas sin hogar en euskadi es de trescientos setenta coma seis euros al mes que solo el dieciocho coma cuatro por ciento de este colectivo percibe la renta de garantía de ingresos

por invalidez jubilación o viudedad y un tres coma seis por ciento el paro

lanzaba recientemente la campaña sin techo con derechos para concienciar sobre las más de trescientos personas que cada día duermen en la calle en euskadi una realidad

e inaceptable al menos para los grupos políticos de la oposición de este parlamento recientemente también hemos leído que hallaban dos

una noticia que también nos llamaba la atención sobre esta realidad palpable y hemos leído que el perfil

en euskadi es el siguiente varón extranjero y sin vínculos familiares

en el país vasco de ellas trescientos veintitrés duermen en la calle pese al aumento de plazas en los albergues todo esto

este gobierno no ha hecho todo lo posible todo lo que estaba en su mano

a esta situación hemos observado también una realidad ciertamente inaceptable cuatro de cada diez personas en situación de calle insultos y amenazas y dos de cada diez agresiones ante estos hechos evidentemente no podemos permanecer de brazos cruzados creo que la oposición en este parlamento durante todos estos años no ha estado de brazos cruzados y es evidente también que este gobierno no ha hecho lo suficiente para

a esta situación y esto es lo que viene a plantear en el debate de hoy el grupo eh bildu llama la atención sobre dos

de dos mil catorce y propone instar al gobierno a que tenga en cuenta esas propuestas de resolución y puedan ser aprobadas

los distintos grupos hemos planteado propuestas semejantes insistir en que efectivamente este gobierno no cumple los mandatos parlamentarios

aprobados aquel día de noviembre del año dos mil catorce por lo tanto la pregunta es qué hace el gobierno vasco es suficiente todo lo que hace el gobierno vasco

que no puede hacer más el gobierno vasco teniendo en cuenta la situación económica que vive euskadi y los recursos económicos que disponemos nosotros pensamos que sin duda sí como digo en aquel pleno monográfico del siete de noviembre de dos mil catorce se aprobaron

algunas fueron de upyd otras muchas fueron de otros grupos parlamentarios y lo cierto es que una vez que hemos preguntado al gobierno sobre el cumplimiento de aquel o aquellos mandatos parlamentarios la conclusión que sacamos es que efectivamente este no cumple la inmensa mayoría de aquellas propuestas de resolución que fueron aprobadas en aquel pleno monográfico de cincuenta y cinco resoluciones aprobadas según la respuesta del gobierno vasco están trabajando o han realizado

deja claro que no tienen una verdadera intención de cumplirlas y que de nuevo vuelven a incurrir en un claro incumplimiento de los mandatos parlamentarios

se nos dice reiteradamente que euskadi va bien y que los problemas existentes son menos graves que los que existen en el resto de españa que tenemos una buena sanidad

y un buen sistema de protección social parte de esto puede ser cierto efectivamente la situación económica de euskadi puede ser mejor que la situación económica

y haberlos haylos y son muchos y por lo tanto nuestra misión es llamar la atención sobre todos ellos hay personas a pesar de que

mejor que la mayoría de las comunidades autónomas españolas hay personas que sufren a diario la falta de ingresos la precariedad laboral el paro los bajos salarios la pobreza en sus diferentes versiones infantil energética y la falta también

hay personas en euskadi que viven en la calle y esto en nuestra opinión es algo absolutamente inaceptable necesitamos un gobierno sensible ante estos hechos que disponga de voluntad política para solucionarlos

a día de hoy ha quedado perfectamente demostrado que este gobierno es un gobierno que no tiene voluntad política para resolver estas cuestiones porque no es sensible

muchas veces niega pero que no tengamos un gobierno sensible y con voluntad política no implica que este parlamento se mantenga de brazos cruzados al revés si tenemos un gobierno insensible tenemos que demostrar que la mayoría de este parlamento

y efectivamente este parlamento es sensible tiene voluntad política tiene propuestas tiene ideas y piensa también que este gobierno

a toda esa realidad comparto lo que han dicho los diferentes portavoces que han intervenido y comparto también la transaccional que finalmente se ha firmado es normal que pidamos hoy

este gobierno haga más de lo que ha venido haciendo es normal que este parlamento hoy denuncie que el gobierno vasco ha incumplido otra vez un mandato parlamentario no solamente esas resoluciones veintiuno y veintitrés que tratamos hoy sino la mayoría de las resoluciones aprobadas en aquel pleno monográfico

al gobierno a que remita al parlamento en el plazo de tres meses una estrategia integral para cambiar de raíz la situación de las personas sin hogar a fin de asegurar

y de atención integral a las personas sin hogar en todos los ámbitos de la vida es normal que este parlamento diga todo esto veremos cuál es nuevamente

del gobierno vasco pero en todo caso nosotros no podemos mantener la misma sensación o la misma actitud que tiene este gobierno nosotros somos

a esta situación y por lo tanto es normal que se apoye esta transaccional y que también se inste al gobierno a que de cumplimiento al resto de resoluciones aprobadas

del siete de noviembre de dos mil catorce es decir se celebra un pleno monográfico de estas características tan importante se debate a fondo sobre qué es lo que debe hacer el gobierno para hacer frente a esta situación se aprueban una serie de propuestas de resolución a través de los diálogos y las conversaciones entre los diferentes grupos

meses después más de un año después comprobamos que el gobierno no asume esa necesidad de cumplir ese mandato parlamentario en fin por lo tanto sensibilidad ante estos hechos nueva llamada de atención a este gobierno y denuncia contundente
a su negativa a cumplir los mandatos parlamentarios eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea

el primer hito importante es la negociación y aprobación definitiva del decreto ciento ochenta y cinco barra dos mil quince de cartera de prestaciones y servicios sociales del sistema

y el perfil de las personas usuarias de los diferentes servicios y prestaciones orientados a las personas en situación y riesgo de exclusión además se ha realizado el segundo recuento de personas en situación de exclusión residencial grave importante para tener conocimiento

también además de en las tres capitales este recuento se ha realizado en otros siete municipios como se ha dicho también cinco en bizkaia barakaldo getxo portugalete santurtzi y sestao uno en araba laudio

irún representan en cuanto a población en su conjunto el cincuenta y dos coma ochenta por ciento de toda la población residente en la capv en bi mila hamalau

los resultados del informe y se analizó el contenido de una futura estrategia integral de atención a las personas sin hogar en euskadi con otras instituciones y con otros agentes sociales tal y como se reclamaba por los diferentes

no cabe duda que cualquier herramienta de planificación en el ámbito de las personas sin hogar y de la exclusión residencial grave ha de tener un carácter interinstitucional y

el papel de los servicios sociales en lo que se refiere al impulso y el liderazgo de esta estrategia resulta evidente tal y como se recoge en el artículo seis de la ley

una de las finalidades del sistema vasco de servicios sociales es la de prevenir

y atender las situaciones de exclusión y promover la integración social de las personas de las familias y de los grupos lo que hace conveniente

como un plan sectorial de los servicios sociales tal y como se recoge en el artículo treinta y siete de la ley doce barra dos mil ocho entendemos esta estrategia como complemento y desarrollo del plan estratégico de servicios sociales de la cav esto es una planificación sectorial de servicios sociales de carácter interinstitucional

no podemos olvidar que losmapas territoriales todavía no han sido aprobados que las tres diputaciones forales están en este momento dando forma a los mismos asunto que igualmente está siendo estudiado en el seno de eudel

a nuestro juicio para poder seguir avanzando en la estrategia integral para las personas sin hogar es en estos mapas donde se especificará la ubicación de los dispositivos y los servicios para las personas sin hogar es importante

si queremos que sea un documento realmente útil y eficaz y no un informe más en una estantería

el análisis del marco normativo de los planes de intervención y de las tendencias internacionales desarrolladas en el ámbito de las políticas de inclusión y atención a las personas

se ha realizado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo en relación a la situación de las personas sin hogar en euskadi y al funcionamiento de la red de atención con ello

deberá dar respuesta una eventual estrategia de atención a las personas sin hogar

e imprescindible en la consolidación del sistema vasco de servicios sociales entendemos que la estrategia integral para las personas sin hogar

hasta que no se aprobó el decreto de cartera no ha sido posible avanzar tanto como le hubiera gustado al departamento en la elaboración del plan estratégico para las personas sin hogar porque la atención

y todavía se encuentran pendientes de definir los mapas territoriales por parte de las diputaciones forales donde los municipios también tienen mucho que decir

a nuestro juicio es imprescindible su determinación

sí ya hemos dicho que ya estaban hechos nos ha hablado de unas jornadas organizadas

equivocadas del decreto de cartera el diagnóstico

por lo que le he entendido entonces ustedes lo que pretenden es esperar a que

esté listo para que se pueda seguir avanzando hay que esperar

esté listo entonces no entendemos por qué ustedes en noviembre firmaron con nosotros esta resolución en el pleno monográfico cuando le pedían al gobierno que trajese ese plan en un año

lo que usted plantea en su enmienda a la totalidad perfectamente se podía haber resultado en una pregunta oral

y preguntas orales e iniciativas hemos hecho unas cuantas y hemos traído esta propuesta porque

por eso hemos traído esta propuesta y cuando habla usted de

y cuando ustedes hablan de la ley de servicios sociales nosotros también hemos hablado que aquí lo que hace falta es una atención integral porque mire nadie

hay muchísimas causas hay muchísimos factores y no se soluciona solo con una vivienda que también y es lo fundamental pero es que hacen falta muchas más medidas hay que ver si la gente estas personas que tienen una enfermedad crónica necesitan

si tienen enfermedades mentales si se encuentran solos si están acompañados acompañadas hay que mirar todo eso si realmente se está haciendo una estrategia para que estas personas se reinserten

lo que décimos es que hay que hacer una labor de prevención una labor de prevención con respecto a las personas potencialmente desahuciables y con personas que también están en otros recursos en recursos sanitarios

pero qué vamos a esperar del partido nacionalista vasco si el pasado mes de enero cuando fallecieron dos personas

se apresuraron en salir a los medios para decir que una de ellas había fallecido por atragantamiento no vaya a ser que subamos la media

una persona que vive en la calle que duerme en la calle bajo cero que no sabemos cómo está alimentada que no sabemos con qué está sobreviviendo ni superviviendo

y fallece eso es una muerte natural para ustedes para eh bildu no

sobrevenida por múltiples factores no queremos más planes ni queremos más estadísticas

pero es que ya tenemos bastante tampoco queremos que nos vengan con un plan bonito para meter en un cajón

no queremos un plan con un nombre en inglés y un horizonte estamos acostumbrados a ver no queremos un homeless dos mil veinte ni un

queremos un plan que llegue a todo el mundo y que cuando se haga el siguiente recuento y el siguiente estudio los datos sean inferiores a los que hoy tenemos jaurlaritzak hiru hilabeteko

eta asmoa para terminar solamente les vamos a decir que nos identificamos plenamente con unas declaraciones del señor aburto alcalde de bilbao el anterior consejero de políticas sociales y vivienda y le mencionamos a él porque

el señor aburto hace unos meses aseguró que sería un fracaso que alguien
muriera en la calle nosotras al igual que el señor aburto reconocemos hoy el fracaso eskerrik asko eskerrik asko

nuevamente táctica de este gobierno en escurrir el bulto en echar balones fuera

pero los hechos que constatamos hoy de nuevo aquí es que

los compromisos que adquiere este gobierno no se llevan a la práctica estamos hablando de dos estrategias

de la crisis económica y sus consecuencias en las personas con una especial vulnerabilidad en otras administraciones otros gobiernos han tomado medidas el gobierno vasco tiene herramientas a parte de elaborar planes concretos

y encomiendas especificas de gobierno en relación a dos cuestiones importantes como son la estrategia integral para cambiar la situación de las personas sin hogar y la nueva estrategia de inclusión activa a parte digo de cumplir los mandatos parlamentarios ustedes tienen herramientas la transferencia de las políticas activas de empleo

una oportunidad para incidir directamente en mejorar la situación de las personas que están en situación de necesidad las personas que necesitan itinerarios formativos para conseguir un empleo porque ese es el objetivo

vasco de protección social desde luego ayudar a las personas y en función de la ley

ayudar a las personas con prestaciones concretas

que por cierto y por recordarlo y traerlo también hoy a colación aquí ustedes

los que ponen las cantidades necesarias para cubrir la demanda existente

utilizando a mí me parece enormemente significativo de dónde están las prioridades de un gobierno

que en un escenario en que la gente lo está pasando mal y sobre todo en un gobierno que está continuamente diciéndonos que la prioridad

luego tenemos planes aprobados en esta cámara hace ya

más de un año mucho más de un año hace dos años va a hacer prácticamente

a este gobierno para mejorar la situación precisamente de las personas que están en peor condición

han hecho oídos sordos a esos mandatos por lo tanto yo creo que vale ya de excusas escusas baratas porque quiero decirle señora arregi que me diga que el decreto de cartera de servicios y prestaciones sociales sí ha llegado cuando ha llegado y ha llegado ya hace bastante tiempo quiero decir que es una excusa

diría yo por lo tanto yo creo que basta ya de escurrir el bulto basta ya de no asumir responsabilidades

y asuma sus compromisos porque vemos que a día de hoy en un ámbito tan importante

aprobado estos planes lo cual es muy significativo de la acción de este gobierno y dónde están las prioridades de este gobierno mire si la verdad tampoco lo tiene tan difícil en la estrategia

por el gobierno de españa por el ministerio de sanidad asuntos sociales e igualdad

previsiones y algunas medidas concretas y sobre todo teniendo en cuenta que están diseñadas desde un punto de vista integral y dándoles un enfoque integral pues bueno podrían servir

y más cuando este gobierno no ha legislado y no ha hecho nada al respecto

los deberes y desde luego se ha preocupado de las personas que estaban en esta situación elaborando una estrategia específica para ellas eskerrik asko garrido andrea

pero la verdad yo no queriendo concretar en esos casos que desconozco exactamente cómo y qué es lo que ocurrió sí le voy a decir que ustedes cuando gobernaban en el ayuntamiento de donostia no se negaron a abrir albergues de invierno a pesar de que había anunciada una ola de frio por lo tanto las lecciones

hay que tener valor para dar lecciones a los demás

sobre si nos preocupamos o no de las personas mire al estado donde han estado gobernando durante los últimos cuatro años con mayoría absoluta además cómo está la situación de las personas sin hogar la situación de la protección social en general etcétera y al señor

que el gobierno y que el partido nacionalista vasco no son sensibles con la situación de las personas sin hogar porque no es cierto y sabe que no es cierto eso

permitir y también hablaba de la negativa

pues nada tampoco más lejos de la realidad este grupo está dispuesto a

van a apoyar también no apoyaríamos el punto primero en el cual se habla de los incumplimientos del gobierno una vez más la falta de voluntad política por lo tanto

permite la votación por puntos el punto segundo y tercero tendrán también el apoyo del euzko abertzaleak por lo tanto nada más lejos de la realidad decir que nos negamos a cumplir los mandamientos de este parlamento

de noviembre del dos mil catorce también tuvieron el apoyo de este grupo besterik ez eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaitu denez

presidente andrea señorías salgo a esta tribuna de nuevo para debatir sobre la devolución

de lanbide un problema que afecta desde enero de dos mil trece hasta noviembre de dos mil quince

mil trescientos doce tienen personas dependientes a su cargo

monoparentales y dieciséis mil ciento setenta y uno viven en alquiler de las que casi cobran una prestación complementaria de vivienda esta es la situación que presentan las personas titulares y las familias que están afectadas

de los pagos indebidos de lanbide recordarán ustedes que en septiembre de dos mil catorce lanbide enviaba una comunicación masiva indiscriminada

en la que les reclamaba cantidades cobradas de forma indebida y les instaba al pago voluntario

no se especificaban los motivos concretos que originaban los pagos indebidos tan solo se indicaba la cantidad a devolver y las opciones de cancelación de la deuda

la situación particular de cada una de estas personas que en su gran mayoría están en riesgo de exclusión social y tienen escasos recursos económicos y cuyos únicos ingresos son precisamente las prestaciones sociales los socialistas realizamos pregunta oral al lehendakari

del tres de octubre de dos mil catorce que contestó el señor aburto que en esa fecha ocupaba el cargo de consejero de empleo y políticas sociales el señor aburto reconoció que no pretendían hacer sentir mal a esas personas

para abonar los pagos indebidos de lanbide y creo que desde entonces hasta hoy tiempo han tenido de medirla también reconoció que no lo habían hecho bien y que entendían la alarma social que se había generado y que sin duda el envío masivo de esas cartas

que no se volvería a repetir pero sí se está volviendo a repetir reconoció que se cometen errores porque los programas informáticos no son perfectos evidentemente

y las personas y porque las personas responsables no son infalibles por supuesto

en el sistema de atención telefónica que se indicaba en la carta

es poder empezar a revertir la situación y que los pagos indebidos dejasen de acumularse desde entonces hasta hoy

año y medio el señor aburto con estas afirmaciones reconoció que los pagos indebidos eran responsabilidad de lanbide nadie me lo podrá negar el seis de noviembre de dos mil catorce se debatía en esta cámara una proposición no de ley relativa a los pagos indebidos de lanbide los socialistas llegamos a un acuerdo

con eh bildu que recogía los planteamientos que de forma muy coherente solicitaban las personas afectadas que no piden otra cosa que devolver aquellas cantidades que estén justificadas y que les hayan sido pagadas indebidamente

atendiendo a su situación económica y social y que en tanto

y como el grupo upyd se abstuvo la iniciativa decayó

por lanbide para hacernos partícipes del problema que les está generando la devolución de los pagos indebidos y nos trasladaron a través de un documento

el quince de junio de dos mil quince en la comisión de empleo y políticas sociales aprobándose sin ningún voto la enmienda transada nuevamente por mi grupo con eh bildu en la que se instaba al gobierno vasco a cumplir con lo establecido en el artículo cincuenta y siete del decreto ciento cuarenta y siete barra dos mil diez de la renta de garantía de ingresos y habilitar los procedimientos necesarios

que podría ser de treinta euros atendiendo para ello

de los servicios sociales de base y teniendo en cuenta la situación económica de la unidad de convivencia de manera que las familias puedan llevar a cabo una vida digna y cubrir

escrita de mi grupo aseguraba que estaba desarrollando una circular de nuevas condiciones de devolución de las cantidades indebidas

de posibilidades a las que se puedan acoger las unidades de convivencia para que la devolución no destruya el objeto del sistema de protección que pretende la ley de garantía de ingresos e inclusión social hecho que nos consta los socialistas solicitamos la circular que nos llegó

y esta tenía fecha de veinticuatro de noviembre pero les puedo asegurar que posterior a esta fecha lanbide sigue enviando la comunicación previa al procedimiento de reintegros

posibilitando el pago voluntario señalando el periodo revisado pero sin concretar la fecha exacta

que se adeuda pero sin concretar el detalle de su cálculo ni la justificación así mismo en esa comunicación se dice claramente que si no se está de acuerdo no se debe hacer nada en ese momento y que más adelante lanbide se pondrá en contacto con la persona para iniciar el procedimiento administrativo de reintegro que será notificado con acuse de recibo

que contendrá la información detallada sobre el posible pone cobro indebido no pone prestación indebida pone cobro indebido cuando eso es incorrecto es un pago indebido en muchos de los casos en algún otro igual no pero en la mayoría son pagos indebidos

oportunas en los plazos establecidos estas personas señor consejero acuden indefensas y bastante

de referencia y usted me consta que lo sabe donde se les indica que si no están de acuerdo

a que se inicie el procedimiento administrativo de reintegro para presentar sus alegaciones cuando reciben la resolución estas personas comprueban que esta es idéntica a la comunicación previa

entre tal y tal fecha sin especificar el detalle de su cálculo ni la causa ni la fecha concreta situando a las personas afectadas nuevamente en una posición

se correspondía con lo que legalmente les pertenecía

es una carta que ha llegado a una persona recientemente

evidentemente yo he tachado los datos que son confidenciales pero esta carta se la

de la cámara y evidencia que lo que yo estoy relatando coincide con lo que aquí pone y esta carta es de una persona que trabaja y complementa sus rentas para poder mantener a sus dos hijos sus rentas de trabajo y que no le sobra ni un solo euro

llegar a fin de mes y esta persona sí quiere pagar pero quiere acceder a esa cuota social personalmente he tenido la posibilidad como representante del grupo socialista de poder derivarle a un

no sabe ni a lo que se enfrenta entonces entiendo que esta es una cuestión que ustedes tienen que entender que los pagos indebidos existen

tiene la obligación de recuperarlos pero también tiene la obligación de saber a quiénes se están dirigiendo y me consta que usted señor consejero sabe lo que estamos hablando y que tiene voluntad pero es decir este tema ya lleva mucho tiempo

visto obligados a traer de nuevo una proposición no de ley a este parlamento porque

ni con lo que recoge ni siquiera el artículo cincuenta y siete del decreto ciento cuarenta y siete barra dos mil diez

que dice que hay que establecer los diferentes tramites que hay que seguir previos a la resolución

entre los que se encuentra el trámite de audiencia previa y eso no se está dando señor consejero también hay que informar a la persona afectada

y prestación complementaria los motivos la cuantía y el periodo concreto y eso tampoco se está dando señor consejero sí que se está facilitando a las personas afectadas

acogerse a una defensa real y efectiva formulando las alegaciones que estimen pertinentes pero muchas de esas personas no

si quieren presentar una demanda en el contencioso administrativo desde bizkaia y desde gipuzkoa se ven obligados a venir a vitoria y usted también eso lo sabe y sí que se está aplicando los plazos previstos

afectadas y eso es muy fácil de saber eso es muy fácil de saber porque lanbide tiene toda la documentación

vuelvo a decir no se está dando la posibilidad de momento de que dicho reintegro se haga mediante una cuota social y me consta porque esta carta tiene fecha reciente dieciocho de enero de dos mil dieciséis

es causa imputable exclusivamente a lanbide señor consejero por ese motivo le vuelvo a decir hemos traído a debate este tema he de decir que hemos

únicamente nos ha contestado ha sido eh bildu y sí que es verdad que el grupo nacionalistas también nos ha dicho de apoyarlo pero no me corresponde a mí decirlo le corresponde a su portavoz cuando le toque su turno de intervención a nosotros nos gustaría en este tema poder ponerle

definitivamente porque hay muchas personas de verdad que tienen voluntad de devolver ese dinero que eso es mucho pero tienen también la voluntad de hacerlo

de acorde a su situación económica porque evidentemente son personas que muchas de ellas viven de las prestaciones sociales y de los complementos de sus rentas de trabajo el acuerdo que hemos firmado señor consejero insta al gobierno vasco al cumplimiento inmediato y sin dilaciones de la proposición no de ley aprobada el quince de junio de dos mil quince

asimismo a que atendiendo a la legalidad vigente y teniendo en cuenta la situación económica de las personas y las familias

y para que puedan llevar una vida digna y cubrir las necesidades básicas

que minimicen los efectos de las devoluciones de las prestaciones percibidas indebidamente y que se establezca esa cuota social de devolución mensual de treinta euros para que las personas afectadas puedan acogerse salvo que estas acuerden con lanbide una solución provisional más beneficiosa asimismo el parlamento insta de nuevo al gobierno

cumplimiento al resto de los puntos de esa proposición no de ley aprobada el quince de junio de dos mil quince también

no se sigan produciendo pagos indebidos en lanbide y en concreto que cree un cauce de relación con agentes sociales y plataformas de afectados y afectadas

de manera inmediata y adecuada a este y otros problemas relacionados

de lanbide por nuestra parte solamente decir que este es un problema que afecta a muchísimas personas que son personas de unas características concretas

y desde luego que el gobierno se debe comprometer a través de su grupo parlamentario

porque me consta señor consejero que hay mucha gente que está dispuesta si es necesario

behar dela eta eztabaida honetan honi buruz hitz egiten ari gara no es la primera vez que hablamos de pagos indebidos que no cobros indebidos decía que es importante tener clara la distinción cuando hablamos de pagos indebidos estamos hablando de irregularidades

y no a los cobros indebidos que son cantidades que no se han cobrado adecuadamente y que son irregularidades que pueden ser imputables

abusivas por lo tanto cuando hablamos de pagos indebidos estamos hablando de

que vienen producidas por el mal funcionamiento de lanbide y por lo tanto son responsabilidad de lanbide y como decía son ejemplos claros de la mala gestión de lanbide a tenor de respuestas a preguntas formuladas por este grupo ya hemos tenido constancia de que estas cantidades son muy muy importantes

estamos hablando de cantidades que llegan cerca de los noventa millónes de euros ya digo de acuerdo a los datos oficiales que ha proporcionado este gobierno

de lanbide y desde luego la necesidad de mejorar la gestión de lanbide para

también hemos constatado a lo largo de numerosos debates en esta cámara no solo este

en relación al plan de trabajo fijado en dos mil trece y tampoco en relación

creemos que cuando hablamos de cobros indebidos queda de nuevo en evidencia el fracaso de lanbide

cuestión que desde el grupo popular hemos denunciado en reiteradas ocasiones y también hemos puesto encima de la mesa numerosas medidas para intentar mejorar este

en cuenta la ingente cantidad de recursos económicos que se destinan en concepto de renta de garantías de ingresos prestación complementaria de vivienda y ayudas de emergencia social

millónes de euros por lo tanto viendo

de las actuaciones de este gobierno vemos qua ha habido una incapacidad

que tiene encomendados lanbide ha habido propuestas concretas en relación a que se cumplan los plazos

en esta iniciativa de hoy estamos hablando de los pagos indebidos que son desde luego expedientes que no han sido resueltos de forma adecuada en otras ocasiones hemos

muy baja y muy lejos de los objetivos de ese cinco por ciento que se fijó el gobierno en

necesidad de reforzar todo lo que tiene que ver con la formación los itinerarios formativos y la empleabilidad de las personas que están

de esta mañana que la transferencia de las políticas activas tenía que haber sido una oportunidad

las prestaciones económicas previstas en la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social y la empleabilidad y desde luego creemos visto lo visto que

aspecto que es la función primordial de lanbide su actuación ha dejado mucho

patente la necesidad de mejorar lanbide en aras a subsanar esa deficiente gestión de los recursos públicos que se han hecho en aspectos

nosotros a la iniciativa propuesta no hemos tenido ocasión de participar en la transacción también lo tengo que decir se nos ha dado una transacción ya elaborada y

anteriormente pero nosotros dado que es un mandato parlamentario no nos vamos a oponer

y sobre todo porque entendemos que aunque podíamos introducir algún matiz sobre todo en el tercer párrafo en donde se habla de la cuota de los treinta euros

que sería mejor atender la situación personal de cada una de las personas afectadas pero viendo

un mandato parlamentario obviamente y ya aprobado en esta cámara no vamos a votar en contra a nosotros

gerta ez daitezen por lo tanto son dos puntos concretos los que planteábamos en nuestra enmienda de transacciones que de alguna forma entendemos

que es que se adopten medidas dentro de la legalidad vigente para atenuar los efectos de los pagos erróneos realizados por lanbide

de lanbide y que han tenido que sufrir obviamente personas concretas

para que no se sigan produciendo pagos indebidos ocasionados por el mal funcionamiento creo que esto es también una cuestión importante porque hay que ir a la raíz del problema y ver por qué

entendemos que hay aspectos manifiestamente mejorables y por eso

intenten mejorar el funcionamiento de lanbide y sobre todo para que cumpla de una vez por todas los objetivos que tienen encomendados de acuerdo a la legalidad vigente

se instaba al gobierno a una serie de cuestiones que son importantes recordar y algunas de ellas

se han recordado ya la primera es que

y sobre este tema hemos hablado también en este parlamento largo y tendido en relación a la relación de puestos de trabajo y todo su desarrollo cuestión que a día de hoy

el segundo punto era cumplir la normativa en cuanto a los trámites de audiencia de plazos de argumentos razones motivos

de las cantidades y por último aquí hemos hablado fundamentalmente

de fijar una cuota social de treinta euros pero se decía más que eso

en esa proposición de ley se pedía la suspensión del pago

aplazamiento de la devolución de cantidades o fijar una cuota social de treinta euros mensuales

afectada e informe de los servicios sociales de base y evidentemente teniendo siempre en cuenta la situación de cada persona y el asegurar que

básicas esto fue lo aprobado en su totalidad y durante todos estos meses hemos estado a la espera

en los medios de comunicación recuerdo como el director de lanbide anunció en noviembre

aplicación pero no ha sido así estamos en febrero de dos mil dieciséis y durante todo este tiempo cientos de personas han continuado sufriendo las consecuencias

esa situación conocemos muchos casos no voy a repetirlos ni los voy a decir pero todos y todas

sí gracias presidenta creo que los portavoces que han intervenido hasta ahora han explicado perfectamente de qué estamos hablando y cuál es el problema no resuelto por parte de este gobierno y está perfectamente explicado también en la justificación de la socialista que nosotros en general compartimos motivo por el cual no presentamos ningún tipo de enmienda compartimos por lo tanto los argumentos y compartimos también la propuesta que se plantea al menos el espíritu de ella desde luego no es un tema nuevo estamos al final de la legislatura y es lógico que determinados temas se vayan repitiendo especialmente aquellos asuntos que tratan de problemas que este

pues no termina de resolver lo cierto es que este tema se debatió por primera vez en noviembre de dos mil catorce la polémica o mejor dicho el problema comienza con el envío masivo durante el mes de septiembre de dos mil catorce

y de la prestación complementaria de vivienda reclamándoles ciertas cantidades de dinero que supuestamente habían recibido de forma indebida durante los años dos mil doce y dos mil trece que suponían unos cincuenta y seis millónes de euros upyd también en ese momento realizó una interpelación al consejero este tema sacó las deficiencias del funcionamiento de lanbide más allá por cierto de que algunos aprovecharan estos hechos

y también aprovecharan para criminalizar a determinados colectivos especialmente a colectivos de inmigrantes

del pago de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda a través de lanbide

considerable se produjeron colapsos en las oficinas retrasos en las citas errores tensión en las propias oficinas empleados saturados y ciertamente con una carga de estrés importante que ellos mismos denunciaron a más del quince por ciento de los perceptores de la renta de garantía de ingresos y prestación

cobrar lo cual es evidentemente responsabilidad de este gobierno y se le reclama por ello la devolución a unas personas que en muchos casos tienen como única fuente de ingresos

reconoció en sede parlamentaria las deficiencias del funcionamiento de lanbide los errores cometidos y llegó incluso a pedir disculpas pero hace falta algo más que pedir disculpas cuando uno forma parte de un gobierno hay que asumir compromisos y hay que poner los medios para corregir las deficiencias de eso se trata cuando uno es consejero de un gobierno y en este caso cuando es del gobierno vasco la estructura de lanbide no estaba preparada para asumir de pronto una prestación tan compleja y amplia como el pago de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda y las consecuencias las pagaron las personas más vulnerables de nuestra sociedad el último debate se produjo de dos mil quince y como aquí se ha dicho los distintos grupos presentamos en aquel debate los mismos argumentos que estamos defendiendo hoy aquí los que

en nuestro caso presentamos en su momento en aquel debate una enmienda de totalidad cuyo espíritu mantenemos hoy proponíamos instar al gobierno a garantizar que lanbide disponga de todos los medios materiales y humanos necesarios para poder

y la prestación complementaria de vivienda proponíamos instar al gobierno habilitar procedimientos flexibles fraccionamientos de pago aplazamientos y cualquier otra fórmula que minimice los efectos que va a tener para las personas que han sufrido los pagos indebidos realizados por lanbide de devolverlos estos procedimientos decíamos deberán ser pactados con los perjudicados por la incorrecta gestión de lanbide y proponíamos también en aquel

en ningún caso supusieran una cantidad superior al diez por ciento de la prestación

hubiera encontrado trabajo el diez por ciento de su sueldo neto mensual formulas evidentemente discutibles pero que en todo caso ponían encima de la mesa la necesidad de que asumiera los errores cometidos y facilitara la devolución de esos pagos indebidos a personas ciertamente en situación muy complicada

una enmienda en la que plantea algo creo que es interesante instar a lanbide a que adopte

por su mal funcionamiento es decir ir a la raíz del problema hacer que lanbide funcione bien de una vez creo que de esta forma resolveríamos problema antes de que estos problemas pudieran surgir

no basta con tener competencias además de tener competencias hay que ejercerlas correctamente

es básicamente la misma enmienda transaccional que ya salió aprobada en aquella comisión de junio del año dos mil quince en aquel momento nosotros votamos a favor

al punto tres nos abstuvimos como el partido popular y como el partido nacionalista vasco pero en todo caso salió adelante hoy se vuelve a plantear

mantenemos las dudas en relación a la cuota mensual de treinta euros pero compartimos el espíritu de la transaccional tenemos dudas en relación a si tienen que ser treinta euros o más pero en todo caso compartimos el espíritu de la transaccional se trata como digo de denunciar también por cierto los incumplimientos de este gobierno uno más el que tenemos encima de la mesa y además facilitar de esas cantidades a esas personas que se encuentran en una situación económica muy complicada por lo tanto no tendríamos ningún problema en apoyar la transaccional

incumplido por el gobierno vasco nos encontramos ante una nueva muestra de insensibilidad de este gobierno vasco nos encontramos ante otro problema no resuelto por este gobierno vasco se acumulan los problemas no resueltos y los incumplimientos pero este gobierno como pueden ustedes observar está cómodo y tranquilo no tiene

no en fin se les ve que estén preocupados por la situación que estamos tratando en este segundo punto de la misma forma que tampoco estaban preocupados por el asunto que hemos tratado en el punto anterior basta con observar al consejero basta con observar

basta con observar qué miembros del gobierno están en este pleno para concluir que este gobierno está tranquilo no tiene ningún problema

los mensajes que les llegan a sus móviles y concluirán que efectivamente este asunto está en fin resuelto en el sentido de que este gobierno

con permanecer vivo y seguramente indolente e insensible graves problemas que acechan a muchísimos ciudadanos vascos en conclusión se acumulan los incumplimientos parlamentarios se acumulan los problemas este gobierno sigue sin resolver los principales problemas de la sociedad pero este gobierno lamentablemente está
muy tranquilo a este gobierno los sustenta el partido socialista eskerrik asko maneiro jauna

desde el día uno de febrero se está aplicando la circular uno barra dos mil quince del director general de lanbide sobre la determinación de las condiciones del reintegro de prestaciones indebidamente percibidas

establece un tratamiento diferenciado basado en si la persona interesada es o no a día de hoy

se puede realizar la devolución en un único pago o mediante compensación mensual en la nómina en este supuesto reciben un tratamiento diferente las siguientes actuaciones si la cuantía indebidamente percibida no fuera por error o fraude de los perceptores se puede elegir

de treinta euros o un porcentaje del treinta veinte o diez por ciento

sobre los que se puede optar en cualquier caso esta postura es más ventajosa para los perceptores que la solicitada en el punto tercero

aprobada en junio y que puede tener encaje en la parte final

que hoy se ha firmado por el grupo socialista y eh bildu si la deuda deriva de la extinción del derecho a la percepción por fraude la única opción de fraccionamiento de la deuda es el treinta por ciento sobre la cuantía máxima de la rgi que pudiera corresponder nik uste dut hori ere bai arrondo anderea zuk

en el resto de los supuestos con carácter general y dependiendo del número

se establecen opciones de importes a compensar de treinta veinte o diez por ciento sobre la cuantía máxima de la rgi que pudiera corresponder

y también una cuota social mensual por importe de treinta euros siempre que se cumplan los requisitos citados en la instrucción y en la que se tiene en cuanto

patrimonio consistente en activos financieros realizables y cantidades dinerarias disponibles estamos hablando

errepikatuko para finalizar decir que lanbide ha establecido diferentes baremos para la devolución de las cantidades

los casos en los que ha habido error de lanbide de los que ha existido fraude o engaño por parte de los perceptores o falta de comunicación de los datos actualizados dando

con opciones a elegir por el o la perceptora a los supuestos en los que el error es consecuencia del funcionamiento de lanbide también

personas con discapacidad o personas dependientes ingresos por lo tanto es evidente que el gobierno vasco ha dado cumplida cuenta de lo solicitado por medio de la pnl aprobada en junio del dos mil quince incluso

y dando un trato más específico a las distintas situaciones ante las que se ha encontrado respecto a las cantidades indebidamente cobradas

sí quiero empezar haciendo una aclaración a la señora garrido que ha dicho usted

palabras textuales no nos han dado la oportunidad de participar en la transacción mire yo no voy a entrar en una discusión ayer a la doce

le envío un correo con la propuesta de transacción a los dos grupos enmendantes es decir

las dos personas iban en el mismo correo y ponía claramente quedo a la espera de la contestación a las dieciocho once vuelvo a enviar una propuesta de transacción

de transacción para mañana después de recoger las aportaciones que me habéis hecho llegar

me contestaron la señora arregi me contestó el señor maneiro y usted misma me contestó a las diez y pico de la noche

en un tema que afecta a muchas personas que reciben prestaciones sociales que tienen hijos

de devolver esas cantidades pero lo único que piden es que se les den facilidades esto es algo muy normal hoy en día que la gente quiera devolver el dinero y que se les den facilidades

garrido blanco y en botella leche y yo no voy a entrar en discusión con usted porque a mí lo que me interesa es que usted esté de acuerdo en que hay un problema y en que bueno desde esta cámara se le demos

dice el señor maneiro que hay que ir a la raíz del problema para que no siga ocurriendo totalmente de acuerdo pero también es verdad que aunque se pongan las soluciones tenemos entre tanto que resolver todo lo que se ha generado en estos años y usted dice que mantiene las dudas en torno a la cuota social de treinta

concretamente se hace referencia al procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidas dice en el caso en el que se estime la existencia de una situación de percepción

la resolución prevista en el párrafo anterior declara la obligación de reintegrar las cantidades que procedan fijando en la misma el plazo máximo del que dispondrá la persona interesada para hacer efectiva dicha obligación así como el número y la cuantía de las devoluciones de carácter mensual a realizar

expresa en otro sentido por parte de la persona titular las cantidades a reintegrar no podrán representar más del treinta por ciento de los ingresos previstos en la persona interesada y de su unidad de convivencia durante el periodo del tiempo en el que se refiere dicho plazo si no tiene que superar el treinta por ciento de ahí para abajo podrá entrar cualquier cuota

la plataforma y espero haberle respondido con toda la educación la misma que usted tiene que es así

dice usted que el gobierno ha estado trabajando para dar respuesta a lo acordado el quince de junio de dos mil quince me consta que existen tres textos de circulares tres el segundo y el tercero y no voy a decir cómo era el primero porque era prácticamente inasumible pero eso es cierto que el gobierno ha estado trabajando

paralelamente estaba enviando comunicaciones a las personas afectadas por este problema

previas a ese procedimiento de reintegro sin concretar la fecha exacta ni la cantidad que se adeuda

decir que lo tengo aquí aquí pone el número de expediente el importe total y el motivo pone

esto es la comunicación y lo mismo pone en el inicio del procedimiento de reintegro de las prestaciones incluso se les dice fecha de pago hombre a mí me diga usted que el gobierno está trabajando lo que tiene que hacer el gobierno es efectivamente trabajar pero demostrarnos que en tanto en cuanto suspende los expedientes

ese tipo de actuación que tiene de comunicación perdone de comunicación previa

que recuperar y bueno evidentemente lo único que voy a decir es que solicitamos que esa circular por favor señor consejero se haga extensiva a todas y cada uno de las oficinas

que se habilite a tal efecto por favor un teléfono de información para atender a las personas afectadas y que si las personas cobran la rgi

y hay un problema que hay algunas familias a las que se les ha extinguido ese derecho por una falta grave de una de las personas de la unidad de convivencia que tienen este problema y sin embargo no entrarían y no tendrían derecho a devolverlo con una cuota social y resulta que no tienen ingresos también quiero que eso tenga en cuenta que las personas por supuesto no vean conculcados sus derechos

interesante que lo pudieran hacer también en bizkaia y en gipuzkoa y bueno también que a pesar de todo nosotros entendemos que las personas

lo que quieren es pagar señor consejero pero lo que quieren es pagar con una flexibilidad acorde a su situación económica yo creo que eso

para asentarnos en lo importante y no en lo accesorio efectivamente manda una serie de correos la señora

estaba el acuerdo con eh bildu y puesto que esta iniciativa no es nueva se ha transado en otras ocasiones y también con eh bildu

y le di las gracias pero como ya lo he dicho que el espíritu lo compartimos y además de alguna forma sí que igual con algún otro matiz pero está introducida la idea del partido popular de que

indebidos imputables a lanbide pues vamos a apoyar la iniciativa y yo creo que

el señor maneiro a raíz de lo que nosotros recogíamos en nuestra enmienda es que esta situación cambie de raíz y mejore el funcionamiento

tiene muchos déficits en su funcionamiento y es manifiestamente mejorable besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

legebiltzarburu andrea al partido popular decirle que

para la devolución de las prestaciones sociales percibidas indebidamente se ha dedicado la mayoría de su tiempo de su primera parte a hablar de irregularidades mal funcionamiento de lanbide tal pero bueno si algo

el mensaje centrado en el fraude que tanto han venido utilizando cuando hemos hablado de este asunto lo cual sinceramente le digo que nos alegra

presentamos hoy tiene relación con la ley dos barra dos mil seis de suelo y urbanismo

y la única que ha habido no fue una ley de gran consenso

de manifiesto cómo agentes implicados tenían y manifestaron recelos y aspectos que no entendían positivos y también administraciones como fue el caso de eudel que puso de manifiesto una serie de

perjuicio para los ayuntamientos independientemente de sus

no tenía en cuenta los tipos de población y la ubicación y las dificultades topográficas

además es una ley rígida y farragosa a la hora de tramitar los expedientes y los procedimientos en esta cámara también se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones

y también se hizo como todos recordarán una modificación puntual en cuanto a la adaptación de los planes

es complejo y hubo una modificación puntual en estos casi diez años de vigencia de esta ley

socioeconómicas han cambiado la crisis ha hecho mella en el sector urbanístico como en otros sectores económicos

de vivienda pues hoy carece de sentido tal y como está redactada

nueva vacía y también usada también en estos casi diez años de vigencia de esta ley se han aprobado

legales que afectan directamente al suelo y la acción urbanística y que hacen necesario la modificación de algunos artículos de esta ley

tanto en la tramitación como en el debate de su aprobación y cuantas veces ha tenido oportunidad

desde nuestro punto de vista en el año dos mil doce el grupo socialista presentó una proposición de ley de modificación de esta ley

en esa proposición de ley ya se apuntaban cambios interesantes y la posibilidad vía enmiendas de corregir aspectos importantes

hace referencia al artículo trece de la ley y a algunos aspectos del suelo la ley

provoque o no elimine ciertos riesgos de desprendimiento o corrimiento en dos mil ocho se aprobó la ley del suelo

obliga a las comunidades autónomas a adecuar su legislación a este nuevo texto de manera que exige la elaboración de mapas de riesgos naturales con carácter previo a los planes generales de ordenación urbana de los municipios

catástrofes naturales que puedan provocar daños materiales y humanos en el futuro nosotros presentamos esa iniciativa en esta cámara

presentaron enmiendas y dado que efectivamente la iniciativa que presentábamos desde el grupo popular hace mención a un solo aspecto

algo que nosotros entendíamos que había que adecuarlo ya desde el dos mil ocho y también la

o entienden que son necesarias en la ley bueno hemos llegado a una enmienda de transacción en el que

un informe donde comparezcan todos los agentes vinculados o relacionados con este sector además de las administraciones

aquellos aspectos que la ley del suelo y urbanismo del país vasco

hoy de aplicación o no resuelven las cuestiones del suelo más bien alargan los procedimientos no agilizan y creemos que es necesario una adecuación por lo tanto hemos llegado a esa enmienda de transacción y es lo que vamos a poner a votación decirles que bueno pues agradecer a los grupos socialista y nacionalistas vascos

mejorar la iniciativa del grupo popular y espero que los grupos no enmendantes voten a favor nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

que estabais aquí entonces lógicamente porque hay unos cuantos nuevos desde entonces aquí

se aprobó una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y socialistas vascos para modificar la ley del suelo y urbanismo

y planes generales a la ley del suelo de dos mil seis para que los municipios que así lo necesitaran pudieran adecuarse a la ley

lotzeko las leyes se elaboran y se aprueban para cumplirlas siempre como es el caso que tratamos hoy

la modificación de la ley siempre es posible es una opción que no hay que descartarla aunque en este momento o en su día como dijo la viceconsejera el gobierno no tenga previsto en su calendario legislativo la revisión de esta ley

siempre se puede mejorar y adecuar a las necesidades del momento lo ha dicho

la situación socioeconómica ha variado ostensiblemente desde que se aprobó la ley y desde que se hizo el último cambio también se deben de corregir sus debilidades concretando sus indefiniciones suavizando su rigidez contemplando sus excepciones

una ley cualquier ley en este caso en esta en su tratamiento y en su ejecución

necesidades que he manifestado

pero tengo que disentir con la señora lópez de ocariz que

entendemos que no la justifican por sí misma porque es un asunto

pero no obstante décimos que existen razones para

digamos retocar o revisar la ley del suelo algunas razón intrínsecas y otras extrínsecas

el paso del tiempo los diez años de la entrada en vigor de la misma y los efectos que ha producido

otra problemática que es a pesar del tiempo transcurrido porque los municipios en euskadi solamente el veinticinco por ciento de ellos se han adaptado a esta ley del suelo tras diez años de su vigencia

que durante este periodo ni siquiera se han utilizado por lo tanto habrá que ver si es necesario mantenerlas

hay otra cuestión también que es la digamos la rigidez inflexibilidad en algunos aspectos de los que ya hemos hablado aquí particularmente en los estándares en materia de vivienda protegida que nos lleva obligatoriamente a

en municipios donde no existe esa demanda lo cual es una especie de contrasentido a nuestro juicio también haría falta analizar

que nos daría alguna pista sobre la bondad o la implicación que este tipo de medidas tendrían con el paso de los años en el municipio respectivo o en otras haciendas en su caso particularmente

las haciendas de las diputaciones de los territorios históricos luego también hay razones de orden

al sector inmobiliario que está directamente afectado por esa cuestión también la

que por cierto señora lópez de ocariz no es el del año dos mil ocho que está derogado sino que es otro del dos mil quince que se ha publicado en el mes de octubre también y hace referencia a la ley de regeneración y rehabilitación urbana que es un escrito que habrá que tratar y finalmente por lo que a nosotros

está la ley de vivienda recientemente aprobada que también contiene determinaciones que afectan a nuestro juicio a la ley del suelo por eso

la necesidad de analizar los aspectos en esta ley

nos parecía oportuno digamos que entre todos hagamos una reflexión sobre los cambios sociales jurídicos y económicos que se han producido en euskadi en materia de suelo y urbanismo

ese informe esas conclusiones se realicen durante lo que resta de periodo de sesiones

y solicito que tanto el grupo upyd como euskal herria bildu se sumen a la misma besterik ez

a casuísticas concretas como karrantza no haya que hacer algún tipo de modificación beraz arrazoia berak

la venda antes del golpe está haciendo un juicio de intenciones de lo que va a resultar de esta ponencia

seguramente no usted es urbanista y seguramente sabe que en todo este proceso de

de que está bien la norma y por tanto no haya que cambiarla puede ocurrir perfectamente como proceso de creación intelectual en la materia a mí me da la impresión de que usted lo que tiene miedo es al debate en esa ponencia sus apreciaciones me han parecido interesantes

del texto legal que merezcan ser modificados en su caso si así nos ponemos de acuerdo la mayoría

sí gracias presidenta la banda

durante décadas y a través de su actividad terrorista trató de imponer su proyecto totalitario al conjunto de la sociedad durante años persiguió de manera

totalitarios con ese objetivo perpetró miles de atentados de todo tipo secuestró a decenas de ciudadanos extorsionó a centenares de personas hirió a miles de inocentes y asesinó a más de ochocientos ciudadanos su actividad terrorista provocó

mujeres y niños amas de casa jubilados trabajadores militares guardias civiles policías nacionales

servidores públicos periodistas profesores universitarios y decenas de ciudadanos anónimos

las injusticias cometidas y las vulneraciones de los más básicos derechos humanos

fueron señalados y perseguidos por la banda terrorista o por sus colaboradores todos ellos merecen el reconocimiento y el homenaje de la sociedad democrática y de los poderes públicos la labor de la universidad y la voz libre y comprometida de los profesores universitarios

en cualquier democracia la labor desarrollada por decenas de profesores universitarios merece un acto público de reconocimiento

expresoy específico que es lo que planteamos hoy a todos aquellos que decidieron ejercer de manera digna su función social en euskadi docentes que salvaron el honor universitario y que manteniendo la dignidad y superando todos los miedos

se enfrentaron con solo la voz y la palabra y su compromiso activo a los postulados y a las amenazas de eta por esa labor que nunca agradeceremos suficientemente decenas de ellos tuvieron que abandonar su lugar de residencia y el lugar donde llevaban a cabo

el gobierno vasco y la upv y todos nosotros les debemos ese homenaje oficial y ese reconocimiento público no tanto por lo que padecieron sino sobre todo por lo que lucharon se trata de recuperar su memoria y su trabajo y de hacer justicia se trata de situarlos en el lugar que les corresponde

en los tiempos políticos que hoy vivimos por lo tanto y en base a todo esto presentamos esta iniciativa queremos que este parlamento inste al gobierno vasco y a la upv a realizar un acto oficial de homenaje y reconocimiento público a los profesores universitarios que durante años se enfrentaron a la banda terrorista eta y proponemos que este acto oficial

durante el primer semestre de este año dos mil dieciséis creo que es buen momento pedirlo ahora que los tiempos han cambiado y que eta ha sido prácticamente derrotada los universitarios que se enfrentaban a eta no solo arriesgaban la vida sino que también ponían en peligro

profesional muchos centenares de profesores se implicaron activamente en la protesta contra la ofensiva terrorista en la universidad firmando manifiestos o dando testimonio activo de lo que estaba pasando nunca han sido reconocidos

específico y expreso y oficial a realizar por la propia universidad que recibe fondos públicos y por parte también del gobierno vasco

y la universidad y eliminar de paso los movimientos cívicos que de ahí surgieron el primer comunicado colectivo de profesores universitarios se publicó

no nos resignamos del dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis que fue firmado por más de ochenta profesores de la facultad de ciencias sociales y de la comunicación

el trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho y presentado en

de bilbao de los trescientos firmantes doscientos eran profesores de la upv entre ellos manu montero

entre otros muchos basta ya como

surge en mil novecientos noventa y nueve apoyada también por un buen número de profesores universitarios que en ese momento determinado decidieron dar un paso hacia adelante

de defender la libertad de expresión los profesores significados

pasaron a ser objetivo especialmente buscado de eta es llamativo que

del parlamento europeo y que sin embargo sus componentes y en general los profesores universitarios que

u otros profesores que pertenecieron a otras plataformas no hayan recibido

en su propia casa en euskadi y un homenaje en concreto oficial y expreso auspiciado e impulsado por el propio gobierno vasco o por la propia universidad

los que vivían amenazando disfrutaban de todas las ventajas académicas y podían optar y ocupar los puestos que la violencia dejaba vacantes otra contradicción los que luchaban eran perseguidos o tenían que irse

recibían ventajas académicas y eran aupados a esos puestos que quedaban vacantes como consecuencia del terrorismo

doscientos cincuenta y tres docentes la época más dura en la upv fue entre mil novecientos noventa y siete y dos mil seis

de aquel momento escribió un artículo mikel iriondo donde decía lo siguiente

el dos de junio un artefacto con cables conectados a una caja vacía fue colocado

decano aparecía en el centro de varias dianas dibujadas en el vestíbulo del centro

a un docente de derecho de san sebastián esto ha ocurrido hace muy poco tiempo y merece la pena recordarlo para homenajear y rendir tributo a esas personas que como digo

en diciembre de dos mil eta colocó en los ascensores de la facultad de periodismo de la upv un

fue desactivado por la ertzantza tras ser descubierto por un escolta

muchos profesores como digo tuvieron que irse

y de la persecución implacable de eta y de sus servicios auxiliares otros se quedaron pero

seguir perseguidos o de tener que ir acompañados de una sitio para otro con escolta sufriendo también

interior y todo esto mientras que determinados alumnos presos de la banda terrorista eta

en fin beneficios académicos de diversos tipos creo que teniendo en cuenta todo esto es el momento adecuado para reivindicar ese homenaje oficial mikel iriondo expresa también y resume piensan muchos profesores universitarios escribió en su momento no hace demasiado que durante los momentos más duros de esta situación yo he notado que hemos sido una molestia

ha escrito recientemente que institucionalmente se han preocupado más de los presos que de nosotros en fin como digo una situación que merece ser recordada y reconocida en abril de dos mil trece año y medio después del cese de la violencia

universidades de fuera del país vasco por las amenazas de eta convocándoles a una reunión para facilitar su reincorporación en su labor docente o investigadora en los campus vascos decía aquella carta que queremos normalizar su situación en la upv una carta dirigida entre otros a manu montero

sara torres entre otros según el rector era hora de acercar las dos orillas del rio

no se observa riesgo alguno que impida normalizar la situación laboral estas personas

por el rector lo cual demuestra también otra vez la insensibilidad del equipo rector que inició esos trámites para pedir a estas personas que volvieran en fin creo que merece la pena también en relación a este asunto denunciar

con profesores temporalmente apartados por razones de seguridad a los que llamó a la normalidad laboral

como si se hubiera tratado de una baja laboral por enfermedad o un largo año sabático y no de un ataque contra los derechos humanos y la propia democracia teniendo en cuenta todo esto nosotros pensamos que es indispensable es necesario pedir a la upv

que lleve a cabo un acto oficial de reconocimiento de todas estas personas que en un momento histórico

como digo decidieron cumplir su deber además de cómo profesores como ciudadanos y enfrentarse al nacionalismo obligatorio en concreto pero sobre todo a una banda terrorista llamada eta y por esto

este reconocimiento oficial de entre las enmiendas que se han presentado se ha presentado una adición por parte del grupo popular que nosotros evidentemente votaremos a favor que propone que en ese acto oficial también se rendirá homenaje a los profesores que impartiendo sus clases en las otras

compartan esos mismo valores lo que sí que creo es que

específico a los profesores universitarios no más homenajes globales al conjunto de las víctimas sino un homenaje oficial y específico a estas personas por la importancia específica que tiene la universidad y que tuvo para enfrentarse

que hicieron mucho para adelantar el fin del terrorismo de eta la pasada legislatura planteamos un homenaje oficial es cierto a los cargos

la pasada legislatura hubo un acuerdo entre el partido popular el partido socialista y upyd para poder desarrollar ese homenaje específico y efectivamente ese homenaje se desarrollo en esta misma cámara y fue un momento histórico que nosotros recordamos con alegría creo que existe

este homenaje específico vistas las enmiendas no saldrá adelante pero en todo caso nosotros mantenemos esta iniciativa

es justa y esos profesores esas decenas y centenares de profesores que se enfrentaron a eta reciben este homenaje no lo han recibido hasta hoy

ha traído a este pleno la propuesta de que instemos al gobierno vasco y a la upv a que realicen un acto público de homenaje y reconocimiento

la iniciativa del portavoz de upyd es consecuencia de la presentación

de un informe elaborado por la europarlamentaria de esa formación

un trabajo que pone en valor el coraje de determinados profesores de la universidad pública también de la de deusto que no se doblegaron al clima de terror que quiso imponer el mundo de eta en los años

la socialización del sufrimiento los socialistas tenemos en muy alta consideración el ejemplo de esos docentes algunos muy conocidos como fernando savater

otros no tanto porque no solo soportaron sin achantarse

sino que siguieron dando testimonio público de su resistencia y fueron

para muchas personas de nuestro país es la misma consideración que tenemos hacia los empresarios jueces fiscales periodistas y demás profesionales

un posible objetivo de los terroristas y siguieron trabajando haciendo de tripas corazón algunos con la molesta compañía de un escolta y otros sin ella

no solo a los profesores universitarios sino a todos los demás colectivos profesionales sin que ello suponga además olvidarnos de los distintos cuerpos policiales

o de los escoltas que velaron por las personas puestas en la diana o de asociaciones cívicas tan dignas de admiración

ciertamente lo que sí es verdad es que estaría más que justificado que la propia universidad del país vasco hiciera un acto de homenaje específico a estos profesores se lo debe sin embargo nos parece que un reconocimiento público e institucional organizado por el gobierno vasco

a un solo colectivo como nos propone el señor maneiro sino que tendría que abarcar a todos ellos y eso por un principio de equidad y de justicia

ni comparar meritos de unos con los de otros y por una razón de eficacia

pero destinados a colectivos diferentes ese es el sentido de la enmienda original que habíamos presentado los socialistas en las que se instaba al gobierno vasco a realizar un acto oficial de homenaje y reconocimiento público a todos los colectivos que durante años sufrieron el terrorismo en el ejercicio de su profesión

continuando en sus respectivas actividades educativas empresariales judiciales políticas o periodísticas ya hemos visto que bildu

todos hemos sido víctimas por igual de una especie de violencias cruzadas y equiparables y que unas se compensan con otras hasta anularse entre ellas en fin en cualquier caso yo creo que tenemos que felicitarnos

vaya a salir adelante a través de una enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo

es muy razonable que puesto que contamos ya desde otoño con el instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos gogora sea este el órgano que se encargue de promover y organizar un acto de homenaje un reconocimiento que encaja por cierto perfectamente entre sus tareas fundacionales

fundamental de gogora según se recoge en la exposición de motivos de la ley por la que se creó este instituto rescatar destacar conmemorar y transmitir los valores y esfuerzos democráticos que en medio de graves episodios violentos pugnaron por defender la dignidad la igualdad y la libertad una definición por cierto que parece pensada ex profeso

porque estamos hablando de ciudadanos que pudiendo evitar convertirse en víctimas callándose o doblegándose ante la amenaza terrorista como hicieron otros en nuestro país

tuvieron la valentía de no cerrar la boca ante la barbarie el coraje cívico de negarse a pagar a los terroristas

de seguir ejerciendo su profesión sin doblar la cabeza motivos más que suficientes para que reciban el homenaje y reconocimiento que merecen por parte de la sociedad vasca

que hoy este parlamento con un importante respaldo político haya dado un paso decisivo para pagar la deuda de gratitud que todos tenemos contraída con ellos

consejero nosotros sí compartimos los planteamientos realizados por el señor maneiro en la presente proposición no de ley en los

muchos profesores universitarios en euskadi sufrieron la persecución

con riesgo para su vida por plantar cara a la intolerancia y por ser claros sobre todo en que eta sobraba en nuestra sociedad dicho desde el foro universitario en las propias aulas

y también en las tribunas periodísticas y sociales algunos tuvieron que acabar abandonando la vida universitaria vasca por la amenaza

presión eta ha sido la causante de mucho dolor

universitaria dentro y fuera de la universidad del país vasco

de la familia de tantas personas vinculadas a la universidad como docentes también como alumnos pero imagínense ustedes el dolor

juan de dios doval profesor procesal en la universidad del país vasco de la facultad de derecho de san sebastián

imagínense el dolor de la familia de francisco tomás y valiente catedrático de la universidad autónoma de madrid y de otras universidades

de manuel broseta catedrático de derecho mercantil en la universidad de valencia

profesor vinculado a las universidades de navarra y de granada hablando de lo vivido señor isasi

asesinatos no los ha condenado ni el dolor

a los que se refiere la proposición no de ley del señor maneiro

todo este dolor de todas estas familias usted hablaba señor isasi hablando de lo vivido yo viví el asesinato de juan de dios doval en la facultad de derecho de san sebastián yo era estudiante en el año setenta y nueve en

al profesor de derecho procesal le mataron ese asesinato de la upv hablando de lo vivido usted no lo ha condenado señor isasi usted no lo ha condenado incluso seguramente lo ha celebrado el informe al que se hacía referencia es un informe interesante es un informe de referencia y yo creo que el informe hablaba de la petición de un homenaje pendiente de un reconocimiento

de otros homenajes de otros reconocimientos pero sí que entendemos que hay una singularidad hay unas características especiales unas referencias que podemos compartir

los profesores de la upv contra eta es claro en él se dice que algunos profesores universitarios lideraron gran parte del discurso contra eta y generaron los más activos núcleos de resistencia ciudadana no fue gratis sufrieron persecución por ellos por eso dice ese informe y nosotros compartimos que la universidad vasca merece una mirada específica pero además los profesores que actuaron con coraje pueden aportar también ahora algunos importantes argumentos para la regeneración de una sociedad que arrastra los efectos de la violencia física y simbólica de eta y su mundo sigue haciendo falta su discurso contra las mentiras contra el blanqueamiento de la imagen de los asesinos

disfrazada con mil ropajes desde luego que lo compartimos y desde luego que compartimos todos esos esfuerzos que han surgido desde la universidad

el señor maneiro el manifiesto de los profesores no nos resignamos de dieciocho de

ese manifiesto fue un paso más allá contra la estrategia del mundo de eta en la universidad más de ochenta profesores de la facultad de ciencias sociales y de la comunicación del universidad del país vasco firmaron ese manifiesto

atonía ante hechos de esta naturaleza no ayuda a solventar en

constantemente alimentado y no solo por las acciones a las que hemos

omisiones no nos engañemos no es un problema que afecta a unos pocos profesores ni un problema solo académico sino que está en juego la aceptación de las reglas democráticas y de las instituciones que emanan de ella también

de los distintos firmantes de ese manifiesto doscientos eran profesores de la universidad vasca de la upv

que también se ha hecho referencia o ese manifiesto de veintisiete de febrero de dos mil dos titulado la verdadera situación de la universidad vasca

a la upv como absolutamente todas las instituciones vascas hay una red mafiosa que apoya justifica y explota el terrorismo en su propio beneficio sin que su colaboración con eta haya sido perseguida como se debe impunidad que explica la larga duración de un fenómeno

pues bien los profesores firmantes de ese manifiesto advertían que la persecución las agresiones y los atentados a los que estaban sometidos muchos estudiantes administrativos y ellos mismos habían obligado a varios de ellos a abandonar la upv y buscar refugio en otras instituciones académicas

vida ese manifiesto hablaba de mafia señor isasi otro

de la universidad del país vasco quiero recordar también las palabras

cada vez que había un atentado o un secuestro decía un grupo de profesores y alumnos

compartíamos el mismo recinto amenazados escoltados violentos e indiferentes

y denunciaba la universidad del país vasco nunca ha hecho nada por retenernos decía a los profesores amenazados ni por ayudarnos a los presos siempre les ha facilitado que estudien en la universidad pero a los profesores decía que te cogieras un año sabático

ahí están las cuestiones son elementos de referencia yo creo que a nosotros nos hace tener argumentos para apoyar la iniciativa que presenta el señor maneiro por eso compartimos que el gobierno vasco quizá pensamos que es él quien

vascos que se enfrentaron al terrorismo y que sufrieron sus consecuencias puede hacerlo yo creo que es una obligación además debe hacerlo nosotros hemos

se reconozca a los profesores que han impulsado la docencia en otras universidades

también hay profesores de otras universidades sin duda que comparten esos valores contra la intolerancia y contra la violencia

nacional de educación a distancia en sus sedes vascas sin duda en alguna que sí además todos conocemos a personas de referencia

esos homenajes de referencia y específicos cada colectivo atacado por eta y el terrorismo

cívicos colectivos pero también propuestas y referencias que es necesario recordar y que es necesario incluso
exaltar con singularidad los profesores universitarios son uno de ellos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

ha sido por tanto un fácil acuerdo porque supone el desarrollo de unas políticas públicas de memoria consensuadas durante mucho tiempo

en una ley que es el producto más potente de un parlamento la ley de creación del instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos

parte de un apoyo a cualquier iniciativa social e institucional pero a ambas a las sociales a las que nacen directamente

de los colectivos de la sociedad civil y también desde las instituciones que promuevan la unión entre las víctimas y la sociedad que pongan en valor la memoria de las víctimas y su testimonio y que lo hagan además asentándose en una reflexión crítica del pasado que nos sirva

en que sea además garantía de no repetición por otra parte

de memoria a través del instituto gogora como no podía ser de otra manera

se insta al gobierno a seguir impulsando actos de reconocimiento a todas las personas

que han sufrido el terrorismo y las vulneraciones de derechos humanos y recogiendo la propuesta del partido socialista instar a un acto a todos los colectivos de víctimas del terrorismo y de violencia de persecución que han sido muchos y diversos en este país y que creemos que desde un acto institucional

reconocidos y puestos en valor todos en su conjunto porque si no corremos el riesgo de como apuntaba el señor pastor dejar a alguien en la cuneta o crear discriminaciones que no tienen justificación en ese sentido creo que la enmienda de totalidad reconoce la importancia de este tipo de actos de este tipo de homenajes e insta al gobierno a que lo realice y

de memoria que ya están poniendo en práctica y

como decía porque han sido muchos y diversos los colectivos que han sufrido el terrorismo y la violencia de persecución y que han dado testimonio y no solamente hablaba de la upv no solamente en la upv y en otras universidades como se apuntaba en los institutos y no solo profesores alumnos que han mantenido la dignidad del valor el reconocimiento y la defensa del valor de los derechos humanos y la postura en contra de cualquier tipo de terrorismo

y que por ello han sufrido en unos casos la amenaza directa del terrorismo y en otras una violencia más sorda

de persecución de agresiones y que no han tenido desgraciadamente la repercusión el eco mediático y en ese sentido el apoyo público

como creemos que nuestra enmienda como suele en ocasiones

es equilibrada es clara y se entiende fácilmente pues creo que

absolutamente justa y necesaria sí señor iturrate se entiende perfectamente bien están en contra de homenajear y reconocer a los profesores universitarios que lucharon durante años contra eta y no nos extraña viniendo de

esa es la posición que ha sido habitual en la historia del partido nacionalista vasco dar

a las personas que han sido amenazadas y perseguidas por la banda terrorista por lo tanto se entiende perfectamente eh bildu el partido socialista de euskadi

quieren un reconocimiento oficial a esos profesores universitarios que plantaron cara a eta este es el resumen del debate de hoy

y homenajes que quieran llevar a cabo más amplios lo que nosotros pedimos es un homenaje específico porque estamos hablando de personas

de la universidad del país vasco y eso es lo que pedimos un reconocimiento específico por la importancia que ha tenido la universidad y profesores de la universidad

por lo tanto en fin más allá de palabrería barata lo cierto es que eh bildu el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco no quieren este homenaje

de dejar alguien en la cuneta no no se corre ningún riesgo no estamos diciendo que no se realicen otros homenajes estamos diciendo que hay una serie de personas de ciudadanos

universidad que se sienten maltratados que no han sido reconocidos mientras los presos de eta pues

beneficiados de determinados prebendas académicas este es el asunto pero ya digo que no me extraña la postura del partido nacionalista vasco podemos recordar que trece días después del asesinato de joseba pagazaurtundua el presidente del partido nacionalista vasco xabier arzalluz acusó de crear un clima a favor de la guerra sucia esa es su trayectoria política por lo tanto cómo van a homenajear a esos profesores que formaron parte

entre otras si en su momento trece días después del asesinato de uno de sus miembros ustedes

dijeron nada más y nada menos que estaban trabajando a favor de la guerra sucia posteriormente se negaron a votar

asesinado por eta esa es por lo tanto su trayectoria y ciertamente pienso que el hecho de que esta iniciativa

no vaya a salir adelante demuestra perfectamente la cobardía ética y moral de gran parte de este parlamento vasco aun reconociendo evidentemente que en el caso concreto y especifico del partido socialista de euskadi muchos de sus miembros o todos ellos han luchado durante años

no pida finalmente a la upv y al gobierno vasco un homenaje específico a estos profesores

evidencia no solamente la cobardía ética y moral de este parlamento de gran parte de este parlamento sino que evidencia también el problema ético teniendo euskadi qué decir de la enmienda de eh bildu que viene a justificar la persecución que sufrieron

habla del conflicto político no hubo en ese caso ningún conflicto político en la universidad hubo profesores que fueron perseguidos y hubo miembros

y de fuera de la universidad en forma de banda terrorista que persiguieron a esos profesores que decidieron no callarse ante los atentados

homenajear a las víctimas y usted y ustedes lo que vienen a proponer es a homenajear o disculpar a los agresores esa es por lo tanto

esta enmienda que ustedes han firmado va en contra de nuestra iniciativa no la mejora es clara porque efectivamente se entiende pero no la mejora ni la completa

que sigue pendiente porque la upv que recibe fondos públicos y tampoco el gobierno vasco no han homenajeado ni reconocido nunca a esos profesores que tanto hicieron contra eta efectivamente esta iniciativa surge de la iniciativa

sobre todo surge de una situación que nos parece injusta y porque estos profesores se sienten maltratados hace algunos años se

entre el partido popular y el partido socialista de euskadi y upyd para homenajear

y ustedes señor pastor no tuvieron ningún problema en firmar aquella iniciativa y llevar a cabo ese homenaje nosotros pensamos que este colectivo también es específico y merece
un homenaje semejante bukatzen joan por otro lado hay otros colectivos que ya han sido homenajeados

han sido homenajeados y están siendo homenajeados ustedes mismos otros partidos políticos homenajean con razón a sus cargos públicos todos los años nos parece correcto específicamente los homenajean a ellos por su trabajo desarrollado

homenaje específico a estos profesores universitarios porque todavía no se ha hecho y porque ni siquiera todavía se ha reconocido

extraordinaria que durante años llevaron

termino leyendo una frase de fernando savater

dice que este informe no habla estrictamente de víctimas aunque algunos padecieron por oponerse a la piara proetarra habla de los profesores decentes que salvaron el honor

del separatismo aún estamos esperando que se le rinda oficialmente el reconocimiento debido no por lo que padecieron sino por lo que lucharon desgraciadamente hay una mayoría es este parlamento que está en contra de realizar ese homenaje y ciertamente

y muy vergonzoso gracias presidenta gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak

sí gracias presidenta sí pues efectivamente como decía el señor isasi

de bildu de acercarse a la enmienda transaccional firmada por el partido nacionalista vasco y el partido socialista y yo quiero agradecer ese gesto pero es verdad que otra vez se han vuelto a quedar a medio camino a nuestro entender es decir

a otro discurso de otros tiempos y yo no puedo compartir con usted que usted para hablar de esa otra mirada y de esa otra memoria personal compare

universitario vasco con el chantaje el acoso la amenaza y la persecución que sufrieron después profesores de esa universidad no son comparables y no son equiparables

ustedes porque si no no avanzaremos de verdad en una verdadera política de memoria

y todas las violencias pero no se pueden equiparar porque no son iguales y moralmente tienen distinta categoría también y señor maneiro siento decirlo pero

que usted nos acuse de cobardes o de no sé cuántas cosas más flaco favor se les hace a quien se pretende homenajear si se empieza por intentar utilizar una iniciativa

nos ha parecido que es mucho más lógico que es más serio homenajear a todos aquellos que sufrieron acoso

y al terror y usted nos pone el ejemplo del homenaje que se rindió en este parlamento pero es que este parlamento era muy competente para homenajear a los cargos públicos vascos amenazados

los que estamos también en este parlamento y nosotros no nos oponemos todo lo contrario a que la universidad del país vasco homenajee a aquellos profesores la universidad del país vasco señor maneiro instemos y yo animo públicamente desde esta tribuna rectores de la universidad a que lo hagan pero hagamos cada cosa donde corresponde si queremos hacer políticas globales de memoria si queremos homenajear a sectores muy importantes de esta sociedad muchísimos más de los que hubieran debido de ser nunca

políticas y donde tenemos oportunidad de expresar y proponer todas aquellas políticas de memoria o criticar las que se hacen pero en todo caso es el foro del que todos

con lo positivo que tiene el que hayamos sido capaces de alcanzar un gran acuerdo político con un muy importante respaldo parlamentario para dar cauce y pedir al gobierno vasco a través del instituto del que todos formamos parte que se realice ese gran acto de homenaje

chantaje o persecución en esta tierra y que por desgracia fueron muchísimos eskerrik asko pastor jauna eh bildutik isasi jauna zurea da hitza

gracias presidenta yo vuelvo a decir que en esta

que estamos acudiendo últimamente en relación con estos temas pero que sí nos parece que podemos hacer esos homenajes específicos

de referencia vuelvo a decir hay muchos colectivos atacados por eta y cada uno con sus características y todos con las mismas pero sí que es cierto que cada colectivo atacado por eta tiene esos valores cívicos colectivos conjuntos

y de referencia en relación con todos y cada uno de ellos pero propios singulares y que es necesario también recordar y exaltar

que eso es posible y que es bueno y que es beneficioso porque los miembros

los concejales los profesores universitarios todos comparten unos valores cívicos colectivos conjuntos pero también singulares y nosotros

hemos compartido el criterio del grupo proponente yo no entiendo la verdad no entiendo

no quieren reconocimiento singular a los profesores universitarios vascos amenazados por eta no lo entiendo no soy capaz de entenderlo

estamos en el parlamento por qué meter a gogora estamos en el parlamento

gogora tendrá que hacer lo que nosotros le digamos que haga el gobierno en su caso y por eso nosotros tratamos de instar al gobierno

gogora es un instituto que tendrá que hacer lo que este parlamento le diga en cualquier caso lo que el gobierno le diga pero nosotros podemos hacer un planteamiento de estas características no sé por qué instrumentalizar algo ahora dará de sí lo que da de sí pero nosotros hacemos un planteamiento exigente

lógico y serio usted ha hablado antes de lógico y serio señor pastor pues yo creo que lo planteado es lógico y serio y tiene que ser

por nosotros desde luego los planteamientos del señor isasi

es decir habla de cuestiones para escaparse de la realidad de la asignatura pendiente que él y su grupo tienen nos habla de todos en este parlamento condenamos

nos habla de las amenazas de la extrema derecha todos condenamos

y en esos compromisos a los que usted aludía señor isasi cuando usted vino aquí se ha olvidado de alguno usted hablaba de compromisos muy generales y desde luego pues planteamientos generales pero usted se ha

de la violencia que llevó a eta a asesinar a un compañero suyo la violencia que el asesinato de juan de dios doval profesor

ese compromiso a usted se le ha olvidado señor isasi es su asignatura pendiente supongo que

espero que les duela yo creo que de momento les fastidia pero si algún día les duele igual hacen una reflexión sobre ese compromiso que usted todavía tiene pendiente
en relación con la universidad en este parlamento muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

bai presidente andrea uno o unos deberíamos estar

por la repetición a las calumnias a las mentiras a las injurias del señor maneiro cada vez que se refiere

muchos de ellos han dado testimonio público durante mucho tiempo desde los orígenes desde año setenta y ocho porque usted hablaba refería en el noventa y seis el primero manifiesto de

en el año mil novecientos setenta y ocho se convocaba la primera manifestación en contra de eta en las calles y se llenó con

a pesar de que por el tiempo parecía que debería acostumbrase uno nunca se acostumbra a la calumnia ni a la inmoralidad

y por lo tanto no nos vamos a poner nerviosos por eso pero sí vamos a seguir manteniendo en pie los mismos principios de defensa de los derechos humanos y de enfrentamiento a cualquier terrorismo o violencia que hemos mantenido mire no es verdad lo que usted ha dicho que el pnv no quiere homenajear a las víctimas el pnv lo que no quiere es bailar el agua a usted ni a su inmoralidad

como hace en muchas ocasiones en buenos y malos en función de su ideología y si es una víctima

del gobierno vasco o en los encuentros de no merece para usted ningún reconocimiento y si son víctimas que además de ser víctimas de eta han tenido una postura beligerante no solo en contra eta sino una postura política en contra del nacionalismo entonces sí merecen homenaje

cuando hablaba de los profesores que decidieron enfrentarse

todo el nacionalismo vasco no solo el que se pretendía obligar desde una postura

por supuesto no el nacionalismo español ese no era nacionalismo obligatorio

al nacionalismo obligatorio y al terrorismo no no el problema es que lo que usted está queriendo poner en valor es quienes enfrentaron al nacionalismo porque aquí

profesores alumnos pero no todos los que se enfrentaron ni profesores ni alumnos ni periodistas ni empresarios lo hicieron comulgando ni defendiendo los postulados del foro de ermua o des basta ya y esos

porque usted está utilizando como siempre las víctimas y el dolor y la lucha contra el terrorismo para hacer ventajismo político el problema su problema es que a pesar de esos esfuerzos

por lo menos el señor barrio ha tenido la decencia de nombrar a profesores que no comulgaban con esos postulados y ha nombrado al profesor

a personas que defienden su ideología y sus obsesiones antinacionalistas mire hablando de trayectorias hacía usted referencia a la trayectoria del expresidente

hay unas cuantas entre los firmantes entre los doscientos firmantes

eta en alguna de sus diferentes ramas o la glosaban o eran prosélitos de eta cuando menos y por lo tanto bienvenidos todos ellos

a la lucha en contra del terrorismo y a favor de los derechos humanos para todas las personas y en todos los lugares pero como

los conversos a la cola por lo tanto lecciones las justas

badago maxima bat esaldi bat deitzen dena filosofian la regla de oro

como te gustaría ser tratado o tratada eta nik pentsatu izan dut

crítica de la razón práctica honen garapena esaten duenean actúa de tal modo que puedas igualmente querer que tu máxima de acción se vuelva una ley universal

de la voluntad de la señora blanco y de eh bildu no nos vamos a oponer a que se vote por puntos nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna

retuvo a cinco jóvenes navarros el dieciocho de enero de dos mil once por orden del juez grande marlaska

estuvieron incomunicados durante cinco días uno de los detenidos patxi arratibel firmó su declaración policial con un galimatías

los agentes no repararon en el gesto tenían lo que estaban buscando lo que necesitaban es decir su autoinculpación

la firma ese galimatías sí que tenía un significado

es laguntza escrito al revés ayuda en euskera

ayuda estando en manos de la guardia civil ayuda ante qué ayuda a quién solicitaba por qué a alguien se le puede ocurrir algo así en qué condiciones se encuentra para hacer algo semejante es realmente la

una declaración emitida de forma voluntaria por qué reclamar ayuda de una manera además que no puedan detectarla

cuál es el mensaje el mensaje se lo explicó al juez grande marlaska cuando fue puesto ante él a su disposición

de esas torturas había extraído un texto una declaración que no reconocía un texto que le obligaban a firmar sin embargo la declaración autoinculpatoria que firmaba

pasaron entorno a un año y medio en prisión preventiva dispersados en diferentes cárceles del estado español

del comité europeo para la prevención de la tortura en mayo de dos mil once el cept hizo público un informe en dos mil trece en el que se puede leer la delegación

alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de las personas con las que mantuvo entrevistas este parlamento conoce este informe porque lo debatimos en este mismo pleno hace dos años y se posicionó ya a favor

para que fueran aplicadas en mayo de dos mil quince el tribunal europeo de derechos humanos condenó a españa por no investigar la denuncia de tortura presentada por patxi arratibel ahora

investiga el caso de otro detenido en aquel mismo operativo xabier beortegi con estos precedentes y a pesar de tener sobre la mesa todos los ingredientes para poner en duda la acusación sobre ellos

enfrentándose a ocho años de prisión por actividades meramente políticas y sociales en el organismo ekin este al que hoy queremos hacer referencia este es el escándalo que hoy traemos a debate testu inguru honetan

gracias presidenta bien para que no quede ninguna duda los socialistas hemos estado siempre y lo seguimos estando en contra de la tortura y de cualquier tipo de maltrato

o reclusas sea físico o psicológico en consecuencia estamos a favor de aplicar todas las medidas que sean útiles para prevenir estas condiciones inaceptables así como investigar cada caso que se produzca y aplicar la ley con todo rigor a sus responsables

un imperativo legal y moral les recuerdo que el artículo quince de la constitución española señala expresamente todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes

el estado español viene obligado a evitar y luchar activamente contra esa lacra por lo tratados y convenios internacionales que ha firmado muy especialmente

de la onu suscrita en mil novecientos ochenta y cuatro hay que decir también porque es un hecho histórico que se han producido en nuestro país muchos más casos de torturas y malos tratos a detenidos que los deseables

y hay que reconocer también que en algunos supuestos también falto diligencia y voluntad en la investigación y que en otros que terminaron en condenas se indultó de forma inadecuada a sus autores y tengo que recordar esto

en nuestro país y sus autores contaran con total y absoluta impunidad

distintas recomendaciones y peticiones para el mejor cumplimiento de los compromisos recogidos en la convención

al que se refiere la iniciativa de bildu expresa algunas preocupaciones y reitera recomendaciones pero también es verdad que el comité también valora los aspectos positivos

del mismo modo que lo es que incluso en los informes sobre los países más cumplidores el comité encuentra siempre algún aspecto que aconseja mejorar

no ha puesto ni va a poner excusa alguna en la exigencia más estricta

al contrario la enmienda que hemos presentado pactado en este caso con el partido nacionalista vasco recoge nuestra posición y nuestro compromiso en esta materia en fin me reconocerá en todo caso señor arzuaga la llamativa la asimetría que todavía muestra bildu en su preocupación por los derechos humanos lo que me lleva a pensar que el énfasis que pone en las torturas que le reconozco que es genuino tiene también otro alcance y objetivo

siquiera un poco el terrorismo de eta en la búsqueda de un relato que equilibre la violencia injustificada y legítima de eta

en su represión ya nos había gustado que ustedes

en el caso de los asesinatos de eta por que el primero de ellos es el derecho a la vida y a la integridad física y tampoco habría estado mal que hubieran reclamado

inhumanos a las personas que mantuvo secuestrada en condiciones

el caso es que en euskadi al menos públicamente nadie ha justificado

pero sí hemos escuchado sin embargo hace unos años a la izquierda abertzale jalear los crímenes de eta

que lanzaban quienes boicoteaban las concentraciones que hacíamos

la tarea de revisar críticamente su pasado de apoyo y connivencia contra el terrorismo nos parece un poco atrevido que se ampare en el comité contra la tortura para afirmar en su proposición lo que el informe de la onu no dice

ni que ampara sistemáticamente a los torturadores y que obstaculiza cualquier denuncia de esa realidad eso lo dice usted no el informe

los socialistas podemos compartir y lo hacemos algunos términos de su proposición especialmente la voluntad de prevenir y perseguir

ni las intenciones que parece que tenía al plantearlos y me alegro

la enmienda transaccional que hemos presentado creo que es un paso positivo que yo reconozco pero los derechos humanos no son algo fraccionable son un todo y no se pueden elegir según lo que convenga a la causa que defiende cada uno y lo mismo pasa con las convenciones de las naciones unidas

una especie de inclinación congénita a desarrollar hipersensibilidad hacia determinadas violaciones de los derechos humanos

mientras se vestían con una especie de piel de rinoceronte para no tener que condenar la violencia criminal practicada sistemáticamente contra el resto por eta hasta que lo dejó y es verdad que hay que exigir respecto a los derechos humanos por supuesto que sí pero todos los derechos humanos para todas

eso es lo que le queríamos decir me quedo con la parte positiva de haber conseguido alcanzar una transacción que me parece contundente y a la vez equilibrada y le reconozco
el esfuerzo que ustedes hacen en esta ocasión para apoyar esta iniciativa eskerrik asko pastor jauna

nobedade garrantzitsuena y no es una mera cuestión

no es una formalidad sin importancia para mi grupo es

a mostrar hoy una postura un pronunciamiento no solo una intervención un pronunciamiento que va a quedar fijado

con una mayoría mucho más amplia de lo que lo ha hecho hasta ahora y yo creo que eso

muy satisfactorio y nosotros además agradecemos al partido socialista la disposición a acordar que por otra parte ha sido

no hemos tardado más que poco tiempo en acordar el texto y creo que el texto es suficientemente claro de cuál es la postura que cualquier partido político democrático y cualquier cámara democrática debería manifestar o deberían pronunciar ante

en este sentido son tres puntos en el primero de ellos el parlamento insta a los poderes públicos a que garanticen a todas las personas detenidas un trato acorde con los derechos humanos y la dignidad de las personas

a todos los gobiernos y fuerzas policiales del estado al poder judicial en fin a todas aquellas personas que están concernidas y

en la guarda de las personas detenidas o reclusas sino también en la guarda y defensa de sus derechos de los derechos que les corresponden

con las normas internacionales y la propia legislación tanto estatal como internacional como

el segundo punto toma en consideración y creo que es importante que el parlamento lo haga de manera formal el informe recientemente publicado no tan recientemente recientemente era en el momento en el que se presentó la proposición no de ley por el comité contra la tortura de naciones unidas

un reconocimiento importante que lo haga y que lo haga además con las mayorías con las que lo va a hacer en el día de hoy y que cumplan las recomendaciones que en este informe se recogen y eso supone un compromiso de los responsables políticos que forman parte de los dos partidos que presentamos

principios y un compromiso de adecuación de las actuaciones

con respeto a estos principios y además hace una cosa más y creo que también es destacable que es expresar

torturas y malos tratos porque como hemos dicho en muchas ocasiones las violaciones de derechos humanos requieren la misma respuesta en todos los casos

y los mismos principios inspiradores en la respuesta de los poderes públicos y en tercer lugar se insta a los poderes públicos a todos ellos a que se comprometan en depurar con todo rigor y diligencia las actuaciones de servidores públicos en este ámbito y especialmente a los jueces y fiscales a que sean especialmente activos

no voy a insistir por tanto en algo que ya hemos repetido en otras ocasiones

incluso el reproche judicial internacional creo sinceramente que cualquier persona o colectivo comprometido con los derechos humanos y con la defensa de los mismos
no solo puede sino debería apoyar esta iniciativa en el día de hoy nada más y muchas gracias eskerrik asko iturrate jauna

sí gracias presidenta upyd condena todas las vulneraciones de derechos humanos upyd condena

la dictadura franquista upyd condena todas las bandas terroristas upyd condena a eta upyd condena

a cualquier tipo de tortura lo hemos demostrado siempre

en el mes de octubre del año dos mil nueve incluso presentamos una iniciativa concreta para hacer frente a esta situación y proponíamos instar al gobierno de españa a impulsar la introducción de sistemas de grabación en todos los lugares de detención

como de los agentes e incluso propusimos instar al departamento de interior del gobierno vasco a aprobar en el plazo de tiempo más breve posible un protocolo que especifique la forma en que ha de practicarse la captación reproducción

de los lugares de detención así como de su registro conservación y acceso precisamente para enviar casos que deben ser evidentemente denunciados por cualquier tipo de demócratas por lo tanto la postura de upyd es clara

democrática ni de ningún tipo para plantear nada que tenga que ver o que proponga algún tipo de medida o de condena a cualquier tipo de tortura usted no tiene ningún tipo de legitimidad para proponer

mientras no condene a eta que ha sido la mayor tortura que hemos padecido en los últimos años en euskadi y lo cierto es que a día de hoy usted

a eta y en el pasado en fin de un modo u otro apoyó su trayectoria criminal por lo tanto mientras no realice ese ejercicio de condenar a eta no tiene ningún tipo de legitimidad usted hablaba de escándalo el escándalo es que haya representantes políticos que

eso sí que es un escándalo y un escándalo todavía mayúsculo y mayor es que haya ciudadanos que durante años hayan apoyado el asesinato de conciudadanos y eso ha ocurrido en euskadi y en el resto de españa durante décadas ese es el mayor escándalo y junto a ese escándalo

de apoyo a eta y su negativa a condenar a eta por lo tanto ustedes no tienen legitimidad para plantear ningún tipo de iniciativa en contra

ustedes tienen que estar callados en relación a esta cuestión solamente deberían poder hablar

para condenar a eta y para pedir perdón espero que puedan hacerlo cuanto antes

buenos días a todos decía usted señor arzuaga que no nos escapemos del tema y que hablemos del tema

pues voy a empezar centrándome en el tema y voy a empezar con una afirmación que probablemente compartamos todos en esta cámara con una condena sin ambages una condena que este grupo ha hecho siempre siempre que se ha debatido un tema similar en esta cámara

nunca nunca bajo ningún pretexto el grupo popular condena y rechaza cualquier práctica de tortura o de maltrato queremos dejarlo bien claro

tolerancia cero y además pedimos y exigimos que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que incurran en estas prácticas de torturas o de malos tratos

solo vale el imperio de la ley la aplicación de la ley y cuando se cometan vulneraciones de derechos humanos todo el peso de la ley tiene que recaer sobre los autores condenamos la tortura como condenamos cualquier violación de derechos humanos pero yo le pregunto

puede hacer y decir lo mismo pueden con la misma contundencia y claridad que hoy traen aquí esta denuncia hacer una condena y una denuncia

violación de derechos humanos ejercida durante décadas por eta puede usted condenar la tortura que eta infligió a tantas y tantas víctimas puede con la misma claridad y contundencia

a la que sometieron a miguel ángel blanco al que retuvieron durante cuarenta y ocho horas y al final

pueden ustedes condenar los quinientos treinta y dos días de tortura a los que eta sometió al funcionario de prisiones ortega lara metido en un zulo

puede condenarla puede condenar que quisieran dejarlo enterrado en vida puede pedir aquí con toda contundencia

que recaiga sobre los terroristas de eta porque además saben cuál es la diferencia entre ustedes

y los crímenes cometidos por eta que nosotros pedimos que a los torturadores se les castigue

se les hacían jefe y la izquierda abertzale los vitoreaba y si no mantenía como sigue ustedes manteniendo

mire como se lo hemos dicho aquí todos para poder denunciar

y para poder denunciar las torturas hay que denunciar todas las violaciones de derechos humanos

se tiene legitimidad porque ustedes lo que pretenden es hacer ver que españa no es un estado democrático de derecho y por eso

durante mucho tiempo eta tuvo que cometer los asesinatos que cometió ustedes pretenden hacer ver que en españa

una práctica habitual y además de querer extender que sistemáticamente se tortura también quieren extender la idea

no se persigue en españa le voy a leer unas afirmaciones la tortura no es un mal endémico de españa no se producen hechos de tortura sistemática en españa estas frases no son mías

pero tampoco fueron pronunciadas por nadie de mi grupo político sino

del comité contra la tortura de la onu manifestó claramente la sesiones

no es la primera vez que traen ustedes a la cámara una iniciativa de este calado

no pretenden denunciar las presuntas torturas y malos tratos las torturas que se hayan podido cometer y que tienen que ser denunciadas en el lugar correspondiente en sede policial

su realidad quede probada que sean castigadas pero su preocupación con esa iniciativa no es esta y no es el cumplimiento de los tratados internacionales no ustedes no tienen

como les decía ustedes lo que pretenden es hacer ver que en españa no es un estado democrático de derecho que es un estado torturador que es un estado que ampara y permite el maltrato que causa sufrimiento

ese es su objetivo poner en cada plato de la balanza un sufrimiento

para ver si a fuerza de presentarlas y presentarlas acaba calando la idea supongo que formará parte del manual de su grupo político de la misma forma que tienen manuales para otras cuestiones como luego haré referencia en españa el uso de los métodos empleados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado está profusamente regulado y en españa como en todo estado democrático de derecho se está sujeto al imperio de la ley

están sujetos al imperio de la ley y están sujetos a controles disciplinarios y jurisdiccionales cuando hay una denuncia el ordenamiento jurídico español tiene contemplado y regulado que órganos administrativos y judiciales que actúan de forma independiente

hablan usted aquí hoy no ha hecho referencia pero en otras ocasiones suelen hablar del innumerable número de denuncias que hay una cosa son las denuncias

después por torturas y ustedes quieren hacer ver que las pocas condenas que no se corresponden con las torturas es porque no se persiguen no

se denunciaba y no es una afirmación sin fundamento

y se decía literalmente que había que decirle al forense que le habían torturado física y psicológicamente y que al juez había que manifestarle lo que usted ha dicho aquí que le manifestaron al juez marlasca que lo declarado en sede policial había sido hecho bajo tortura eso estaba en un manual

acusados del terrorismo de eta por eso el número de denuncias es elevado y no se corresponde con las efectivamente después acaban en condena

hablan ustedes de informes bien pues el informe

de la detención incomunicada y observa con interés en ese momento estaba en trámite

para regular de forma mucho más estricta la detención incomunicada

tortura en su informe señala que la cooperación recibida por parte de la administración española fue excelente que la delegación tuvo acceso rápido a todos los lugares de detención

toda la información solicitada y el relator de la onu para la tortura también señaló que los esfuerzos desplegados por el gobierno de españa

y fomentar la tolerancia y la solidaridad en el trato de los detenidos es de

solicitan ustedes en su iniciativa que se exprese que toda persona que haya sufrido tortura y malos tratos

tenga el derecho a su reconocimiento la reparación y no repetición y recalca el compromiso de poner en marcha medios adecuados y eficaces para su realización

los va a tener por qué porque lo diga el parlamento qué quiere decir que no lo tenían antes

hasta ahora no se ponían esos medios habla de derogar la legislación antiterrorista en primer lugar esa legislación antiterrorista existe porque existe el terrorismo

y quieren hacer ustedes ver que esa legislación específica para delitos de terrorismo

no es así con relación a la legislación antiterrorista tenemos que decir que en alemania

disponen también de una regulación concreta para los delitos de terrorismo tras los atentados terroristas del dos mil once en estados unidos del dos mil cuatro en madrid del dos mil cinco en londres se produce un

desde luego la legislación más dura contra este tipo de delitos no es la española ni muchísimo menos

y le puedo poner después ejemplos con relación a la detención incomunicada como le he dicho se hacía referencia en uno de los informes pero

la ha restringidos solo se puede hacer por autorización judicial de forma excepcional

si son todos algunos o ninguno de los derechos del detenido de los que se va a prescindir con relación a la audiencia nacional señalan que no cumple las garantías procedimentales señalando que tiene conocimientos de torturas y no realiza las investigaciones

y pretendían ustedes que el parlamento aprobase esa afirmación porque eso más que una afirmación

propagandístico porque eso es lo que ustedes traen aquí con

propaganda no sé con qué fines desde luego no sé con qué fines

lo que menos les importa es el cumplimiento de los tratados internacionales y desde luego este grupo no va a colaborar con eso eskerrik asko llanos andrea

en nuestra actitud y yo le tengo que decir que tal vez la asimetría está en el tratamiento que se le está ofreciendo a ciertas victimas

voy a decir profusa por parte de la justicia de la policía de cualquier tipo de ámbito de investigación para otras

cero mientras para algunas hay una verdad hay una justicia y una memoria otras victimas se puede hablar

pero no existen torturados no existen torturadores hay una nebulosa mercedes ancheta manuel tomás antonio goñi

son nombres de personas a los cuales no sean producido una investigación y murieron en comisaría entraron vivos y salieron muertos o murieron en los días inmediatamente posteriores a su liberación

ni conocidas ni reconocidas y es precisamente esa la iniciativa que traemos hoy y es precisamente por eso por lo que nos apoyamos en las recomendaciones de los órganos internacionales para traerla es cierto que interpreto una parte de lo que estos órganos están diciendo y que

y es por eso lo que traía a mi iniciativa y también interpreto que los organismos internacionales deben de estar hartos

que repite exactamente similares recomendaciones para que sean tomadas en consideración

rápidamente por las declaraciones de maneiro porque parece que él es el que marca cuál es la legitimidad democrática qué es lo que se puede decir cómo nos debemos expresar en qué términos

democrático desde su punto de vista pero sí que quiero entrar también

que exige la aplicación para todos igual del peso de la ley lo que pasa es que la ley

cuando nos estamos refiriendo a los casos como los que hoy traigo yo aquí vuelvo a decir

vine una persona y lanza un testimonio dice yo

se le puede creer o tal vez no pero es el comité contra la tortura quien viene a decir que ha sido sometido a un régimen de incomunicación

de todos los detenidos a la asistencia letrada a comunicarse con su representante legal que no ha podido ponerse durante cinco días en contacto con sus allegados a quienes no se les ha informado ni tan siquiera en qué estado se encuentra dónde se encuentra en qué lugar se encuentra no ha podido tener según el comité contra la tortura el acceso a un médico independiente

esta persona tiene un testimonio y las naciones unidas me están dando un marco desde mi punto de vista

que es que han fallado absolutamente todos los mecanismos para verificar

y es por eso precisamente que vamos a apoyar la iniciativa que ustedes traen nosotros poníamos el listón más arriba

que espero al menos que hoy se abra una oportunidad para que podamos empezar

categoría sino de primera categoría que empecemos a conocer

parece que paco etxeberria va a traer un informe en el cual

entradas de personas que dicen haber sufrido la tortura espero que se les pueda reconocer espero que se les pueda

sucedió no volverá a suceder y en un pueblo tan pequeño como este me da la impresión de que

sí da para decir que ha habido un estado torturador y que su práctica ha sido sistemática

sí gracias de nuevo señora presidenta usted ha leído

de algunas personas víctimas de tortura si hubiera tenido que leer los nombres de personas

asesinatos todavía estamos esperando a que ustedes condenen hubiera tardado bastante más es más el señor basagoiti hizo ese ejercicio una vez aquí en esta cámara

el tiempo de la intervención por mucho que ustedes vengan aquí una y otra vez a decir que en españa sistemáticamente se tortura no es cierto

no es cierto que ha habido torturas sí que se tienen que castigar también que condenamos la tortura también y no dice no es el señor maneiro el que dice quién tiene legitimidad o

eso es algo obvio quien condena todas las violaciones de derechos humanos está legitimado para hacer una condena quien hace una selección en la condena quien hace una condena selectiva quien le parece que la tortura que las víctimas

pero las víctimas de eta no sé de qué categoría deben de ser para usted pero ni tan siquiera merecen la condena por su parte desde luego

ninguna y respecto a la enmienda que han presentado

dos acuerdos verdad mire es verdad que lo que dice en esa enmienda es asumible pero también le digo una cosa para condenar la tortura para que este grupo condene la tortura no hace falta votar

una enmienda para seguirle el juego a un asunto

los representantes de bildu nosotros condenamos la tortura

que parecen poner en duda y por eso la van a votar favorablemente parecen poner en duda el compromiso que los poderes públicos de españa el compromiso que todos los demócratas

y parecen poner en duda las actuaciones que está haciendo el gobierno de españa y muchas de esas cosas
como la que se tome en consideración isiltasuna mesedez que se tome en consideración

informe ya ha dicho el gobierno de españa que se está tomando en consideración y miren nosotros no necesitamos hoy aquí presentar una enmienda o votar una enmienda para dejar bien claro que condenamos la tortura

es seguirles el juego a estos señores en esa maniobra continua a la que nos tienen acostumbrados que es a poner en solfa al estado de democrático y de derecho
para eso con nosotros no cuenten eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaitu denez